saca la txartela hasta abajo

está al revés jarrai dezagun

aurre egiteko garaia zuen honezkero recordaba que el veinte de mayo de dos mil catorce el consejo de gobierno aprobó el proyecto de ley de modificación de la ley de gestión de emergencias

que el proyecto de ley llegó a este parlamento después de recibir en su proceso de tramitación aportaciones de la asociación de municipios vascos eudel de las tres diputaciones forales del ayuntamiento de bilbao de la agrupación de voluntarios de protección civil de

por supuesto del informe favorable de la comisión de protección civil de euskadi la ley de gestión de emergencias de mil novecientos noventa y seis fue una norma pionera en nuestro entorno su mérito

único la gestión rutinaria de las emergencias ordinarias y hacer operativa una respuesta urgente ante situaciones de emergencia colectiva y de catástrofes

desde que se aprobó y se hace necesario actualizarla reforzando ese modelo

se trata por tanto de actualizar el sistema vasco de emergencias y de protección civil de reforzar y de optimizar su bondad operativa y su valor

que persigue esta modificación se pueden resumir en tres apartados por un lado

aspectos del sistema vasco de protección civil y de emergencias para propiciar la concertación y la interrelación de las actuaciones de las distintas instituciones y servicios que están concernidos y el rol de la iniciativa social en su complementariedad con el nivel público

en aspectos como la organización de la previsión y de las alertas y en tercer lugar con relación a los derechos y deberes de la ciudadanía establece

de autoprotección y también el régimen sancionador al que dan lugar determinados comportamientos en este sentido el proyecto de ley

a los riesgos de emergencia y a su gestión esto es el derecho a la información el derecho a la colaboración y a la participación también determina los deberes de la ciudadanía ante esas mismas situaciones principalmente

de adoptar medidas de autoprotección preceptivas el proyecto de ley también concreta otros aspectos que afectan a los colaboradores especiales de la protección civil

o qué establecimientos están obligados a disponer de medidas de autoprotección también refiere que los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas de los servicios sanitarios o los de gestión de suministros básicos como puedan ser

afrontar la emergencia y define entre otras cosas el papel que tienen los medios de comunicación social en la difusión de avisos e instrucciones

el contrapunto de estas obligaciones se establece en aquellas medidas excepcionales que la autoridad de protección civil pueda adoptar temporalmente

a las situaciones de emergencia de una manera adecuada y eficaz por otro lado también la modificación de la ley los mecanismos de previsión y prevención previsión y prevención ante situaciones de riesgo de emergencia que se puedan generar en el ámbito de la previsión regula por ejemplo el inventario y mapa de riesgos de euskadi la red de información de protección civil la vinculación del servicio vasco de meteorología euskalmet a la red de información y alerta la existencia de un programa de actuación ante la predicción de vigilancia de fenómenos meteorológicas adversos

urbanísticos tengan en cuenta el inventario y el mapa de riesgos y como consecuencia

de impacto ante eventuales catástrofes en materia de autoprotección

en esta materia esta es una de las novedades así se establece la obligación de disponer de un plan de autoprotección para aquellas empresas o entidades que puedan generar riegos graves o que por su naturaleza puedan ser especialmente

también se prevé que las autoridades de protección civil puedan ejecutar subsidiariamente y a costa de los obligados las medidas de seguridad exigibles a las situaciones de emergencia por otra parte

programar actividades de información de prevención y divulgación en materia de protección civil en los diferentes ciclos formativos y ciclos educativos

ejercicios o simulacros de evacuación y finalmente se refuerza la vinculación con el servicio vasco de atención de emergencias y protección civil de todas aquellas organizaciones que son relevantes para la seguridad bien por su vulnerabilidad o bien

toma especial relevancia en esta modificación de la ley la actualización de la naturaleza y las funciones del centro de coordinación de emergencias de euskadi

el flujo de la información que sea relevante y pertinente para que los servicios intervinientes puedan afrontar la emergencia de una forma adecuada y eficaz a estos efectos el centro de coordinación de emergencias de euskadi

operativas de los servicios de emergencia y seguridad de euskadi y su función principal consiste en ser el centro de coordinación operativa conforme a lo que propios planes de protección civil y las correspondientes tácticas operativas e incluye por supuesto el servicio de atención a las llamadas de emergencia

de la ley contempla un apartado de distinciones y reconocimientos para todos aquellos actos que sean destacables tanto que tengan carácter personal como para reconocer la colaboración ciudadana o aportaciones de otras entidades

dedicado al régimen sancionador un capítulo que no existía en la

su objetivo no es otro que el de reforzar el cumplimiento de la ley de gestión de emergencias conforme a los principios básicos que debe regir el derecho administrativo sancionador

a estos efectos se considerarán infracciones muy graves

el de no elaborar o actualizar los planes de autoprotección el no disponer de un seguro de responsabilidad civil o aquello de impedir una inspección y también se considerarán como infracciones muy graves el acto de comunicar falsos avisos de emergencia que provoquen movilización de recursos

abusivas insultantes amenazadoras o jocosas a teléfonos de emergencia y que por tanto afecten al servicio propio o el hecho de

autoridad competente de protección civil en una circunstancia concreta de emergencia y riesgo por las infracciones previstas en esta ley o en esta propuesta de modificación de la ley del mil novecientos noventa y seis

general de la comunidad autónoma como los municipios o la administración foral siempre dependiendo del ámbito en el que se produzca el incumplimiento institución que ostente la dirección del plan de protección civil que se haya activado en cada momento la ley también contempla otros aspectos relacionados con la organización y las especificidades de los servicios de emergencia que están adscritos al departamento de seguridad

la función de estos servicios de emergencia es la de asistir a sus autoridades en el ámbito de sus atribuciones en las actividades de planificación intervención y coordinación en las situaciones en que se produzcan la emergencia

fue presentado en mayo de dos mil catorce a este parlamento venía con un objetivo el de actualizar el sistema vasco de emergencias y de protección civil y el impulso de reforzar y optimizar su bondad operativa y de servicio a las personas como he dicho en un principio la tramitación parlamentaria

mejorar la redacción del texto aprobado por el consejo de gobierno gracias a la contribución a las aportaciones de todos los grupos

se ha hecho en sede parlamentaria nos consta que el debate ha permitido analizar acordar y aceptar gran parte de las enmiendas presentadas al proyecto y esto como decía es de agradecer del sentido del voto hay que agradecer el esfuerzo común realizado por todos los grupos parlamentarios además de incorporar importantes mejoras técnicas la ley refuerza la estructura de los servicios públicos de gestión de emergencias

clarifica también los modos de participación del voluntariado su formación sus funciones y el reconocimiento a su labor vivimos en una sociedad

están orientadas fundamentalmente a mitigar los riesgos mediante la prevención y la seguridad y a preparar la respuesta

los retos de futuro pasan por implicar al conjunto de la sociedad y afrontar el reto de lograr una sociedad más resiliente una sociedad capaz de afrontar y resistir situaciones de peligro capaz asimismo de recuperarse de sus efectos eficientemente en un

capaz de mejorar su protección futura y capaz de ser solidaria con situaciones como las que viven estos días japón o ecuador y otras tragedias colectivas como son los conflictos bélicos y tragedias como la crisis de refugiados a las que asistimos estos

a estos efectos el proyecto de ley establece la creación de una unidad de apoyo ante desastres con el fin de que profesionales de aquí profesionales de emergencias de

en euskadi sino también que puedan colaborar en misiones fuera cuando se solicite

gracias señora presidenta señor lehendakari miembros del gobierno buenos días señorías buenos días a todos efectivamente señora consejera sí yo creo que después de los trabajos de la ponencia y de la opinión del resto de los grupos va a contar usted con el apoyo para sacar adelante este proyecto de ley desde el grupo popular mantenemos un grupo

pero porque creemos simplemente que mejoran o apuntalan o desarrollan más el texto que de hecho desde inicio consideramos que era un texto bueno un texto

con ese interés de mejorar el texto si bien no estamos en contra de radicalmente de lo que queda fuera de nuestras enmiendas salvo en una parte que comentaré más adelante sí me gustaría en primer lugar alabar y digo alabar con todas sus letras el ambiente de trabajo de la ponencia creo que desde el señor

en esta ponencia su forma de trabajo su forma de hacer las agendas la de facilitarnos a todos los demás el espíritu abierto para admitir todas las ideas del señor unzalu

un trabajo cómodo un trabajo fácil y al final está un texto acordado prácticamente por

entre todos los grupos de las enmiendas que nosotros dejamos para su votación hoy quería destacar

de alguna manera puesto que este es el turno de la defensa de las enmiendas aunque ya sé me parece que me han dicho que no me van a aprobar ninguna

a domicilio o cuando se pudieran identificar aspectos de ilegalidad en los expedientes sancionadores esa comunicación también a los órganos judiciales competentes la utilización previa para los ejercicios prácticos de gran envergadura en caso de emergencia

a este parlamento no para su debate lógicamente sino para su conocimiento dejar bien claro en la ley también esto sí me parece muy importante ya lo hicimos en su momento

se nos consultó esta norma como diputación foral de álava la existencia de

que existen otros en otras administraciones que pueden a futuro existir alguno más y que sería necesario que queden recogidos en la ley simplemente por seguridad para su existencia y funcionamiento

merecedores de esas sanciones y la clasificación de las mismas o la cuantificación de las mismas

dejando al órgano sancionador la libertad para que algunos pequeños comportamientos que no sean de gran importancia

castigados con esa sanción mínima de los ciento cincuenta euros respecto de las enmiendas que el grupo eh bildu mantiene para su debate nosotros vamos a votar

en la ley y en la parte del salvamento marítimo porque constatamos que no es el lugar para hacerlo puesto que de la misma manera tampoco hemos regulado en esta norma ni el proyecto nos traía de la redacción original del gobierno la ordenación de los servicios de emergencias de canarias

u otras cuestiones que no son competencia de este parlamento y para evitar precisamente que nos encontremos con recursos judiciales que luego nos quejamos mucho de que presentamos cosas

y acaban en los tribunales pues para evitar esas cuestiones entendemos que

en la forma en la que se pretendía regular con sus enmiendas no corresponde a este parlamento porque no son nuestras competencias al final de la tramitación de la norma nos apareció una disposición final segunda

yo creo que con muy buenas intenciones la creación de esta escala de emergencias la modificación de la ley uno barra dos mil cuatro que es necesaria es cierto pero que no es el sitio más adecuado y por eso vamos a pedir la votación

entre los textos no enmendados como ya le he comentado a la presidenta antes del inicio del debate creo que no es el sitio más adecuado porque no se ha consultado

porque de hecho no lo incluyó en origen en la redacción del proyecto que se trajo a esta cámara porque su sitio podría ser bien el estatuto del empleado público

pendiente de comenzar la ponencia en esta cámara o bien la ley de bomberos que ya ha comenzado serían los lugares más adecuados teniendo en cuenta

se ha aceptado efectivamente incluirlo aquí que no pinta nada pero bueno

a abstener en esa disposición puesto que lo que no se ha hecho es consultar precisamente ni a las

ni siquiera se ha consultado a los representantes de los trabajadores sobre cuál es su opinión en esta creación de esa escala si es la correcta si no es la correcta

en esta norma de emergencias y por eso queremos dejarla y no quisiera salir de la tribuna hoy sin volver a comentar el buen ambiente de trabajo que ha habido

la facilidad que se ha dado desde el gobierno para admitir las transacciones las propuestas de todos los grupos y yo creo el buen texto que va a quedar lo que me sorprende es que sabiendo si es fácil conectar las agendas de todo el mundo para reunirse para sentarse a trabajar si es sencillo

dedicar muchas horas de trabajo con el auxilio lógicamente de los letrados de la cámara para llevar a cabo el proyecto conociendo esa receta y siendo muchas las necesidades de los ciudadanos lo que no entiendo es por qué es tan baja
la producción legislativa de este parlamento muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

por lo tanto y para resumir en una palabra la valoración que hacemos de la reforma de ley de emergencias podemos

por una parte estamos contentas estamos contentas por haber conseguido abrir camino a cuestiones que considerábamos importantes y básicas como

del funcionamiento y coordinación de las emergencias como la estructura organizativa pública de emergencias la formación la red de voluntariado y por otra parte estamos disgustadas por haber perdido

de dotar a emergencias de estructuras en las cuestiones diarias mediante planes o protocolos y porque otra vez más pues el salvamento marítimo queda en tierra de nadie eskerrik asko

eta jatorriko testua hobetu dela ponentzian egindako lanari esker el trabajo que hemos hecho en esta ponencia ha sido intenso

que nos ha llevado a un consenso amplio en este sentido quiero

ese espíritu constructivo de todos los miembros de la ponencia estaba claro que todos y todas teníamos que hacer un esfuerzo en relación con algunas cuestiones pero ese es el trabajo parlamentario en estado puro las enmiendas que presentamos los grupos parlamentarios pasan por ese taller que es la ponencia

porque sirve para pulirla sirve para acordar y sirve incluso para pactar las discrepancias en definitiva sirve para avanzar

normativos de estas características es por ello que en este caso no puedo hacer mía la célebre sentencia del político y estadista prusiano

con las leyes pasa como con las salchichas que es mejor no ver cómo se hacen el texto pactado actualiza todo el sistema vasco de emergencias y protección civil y aporta una perspectiva integral que permitirá ofrecer la previsión y la respuesta adecuada que deben tener las emergencias

este parlamento aprobó una ley pionera que organizaba un esquema de interacción y coordinación interinstitucional ante todo tipo de catástrofes partía de la experiencia que arrancó con las inundaciones de mil novecientos ochenta y tres

aprendimos lo importante que es añadir cabeza al corazón solidario que actúa con entusiasmo

protocolos y sistemas expertos de previsión que indicaban cómo podrían evolucionar catástrofes tales como incendios o inundaciones pero también es verdad que en estos veinte años

y en el tiempo transcurrido desde entonces se han producido muchos avances que facilitan una mejor gestión de las emergencias

instituciones pueden dar a una situación de riesgo así se consolidan

regulando la red de alertas y vinculando los servicios meteorológicos con la protección civil la ley contempla otras muchas cuestiones de calado

ante situaciones de emergencia todo lo relativo a la formación y al voluntariado renueva el régimen sancionador y actualiza las funciones de los centros

entre otras cosas porque la consejera ha hecho un buen repaso de la norma y ha expuesto los elementos destacables de esta ley que hoy aprobamos

euzko abertzaleak quiero expresar nuestro agradecimiento al trabajo del gobierno vasco en general y del departamento de seguridad en particular ya que nos envió un buen proyecto que en la ponencia hemos tratado obviamente

ha hecho un esfuerzo de pacto en la defensa del proyecto enviado por el gobierno y votará

por la ponencia y el dictamen de comisión ahora bien considero que lo reseñable hoy aquí y también lo ha señalado la consejera es la puesta en común

como esta de las emergencias de los grupos que representamos a la sociedad vasca fruto de esa aproximación y ese trabajo ha llegado este consenso

en ese empeño se han aceptado o transado todas las enmiendas del grupo socialista

de las cuarenta y nueve enmiendas del grupo popular con eh bildu se ha transaccionado cuatro de sus ocho enmiendas y por último está upyd que ni ha presentado enmiendas ni ha acudido a la ponencia de una o de otra manera

el hecho de que hoy votemos que no a las enmiendas que el grupo popular y eh bildu mantienen no significa para nada que el consenso se rompa sino que en ese consenso han quedado lógicamente disensos puntuales que no restan al acuerdo principal porque no me cansaré de repetir que la ley ha sido mejorada gracias a la voluntad de todos los grupos y en ella se recogerán enmiendas de todas las formaciones hemos acordado con todos y entre todos

en cualquier caso y en definitiva como portavoz de euzko abertzaleak

el trabajo realizado y congratularnos conjuntamente

gerorako utziko dugu la segunda votamos luego bozkatu dezakegu

legebiltzarkideok egun on guztioi brevemente para explicar el voto de los socialistas vascos que acabamos de apoyar la aprobación

de gestión de emergencias porque pensamos que es una buena ley para la ciudadanía incide en la cooperación y coordinación de los servicios que han de intervenir en situaciones de emergencia otorga al gobierno vasco la facultad de dirigir esa coordinación y cooperación con una estructura organizativa pública profesional se avanza en las medidas de prevención

de policía y emergencias la preparación de los agentes que han de intervenir en las situaciones de emergencia y muchas otras medidas que pueden suponer que la ciudadanía vasca

por otra parte hemos propuesto la inclusión de la creación de la escala de emergencias precisamente porque consideramos que es una reivindicación antigua ya reflejada en la modificación que se envió a esta cámara en el año dos mil doce y que las otras posibilidades de incluirlas no tienen visos
de ser aprobadas mesedez isiltasuna ni siquiera a medio plazo

de la poca diligencia que han tenido el actual gobierno y el grupo que lo apoya en la gestión de la producción legislativa hemos aprobado este proyecto de ley con una doble satisfacción la primera porque el texto aprobado es prácticamente una copia casi literal del que envió esta cámara

que a pesar de haber dormido durante meses en el limbo de los justos por fin ha podido ver el proyecto original no pudo aprobarse a pesar de haber superado el periodo de enmiendas

el actual gobierno tardó casi dos años hasta septiembre de dos mil catorce para remitir a este parlamento su proyecto que repito era una copia casi literal de la anterior al cual ni siquiera se habían incorporado prácticamente ninguna de las casi cien enmiendas que había presentado el grupo nacionalistas vascos en dos mil doce la novedad más importante del texto remitido en septiembre de dos mil catorce

que es el que se refiere a los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento con la justificación de que estaba previsto enviar a esta cámara un proyecto de ley específico cosa que ocurrió un año más tarde en septiembre de dos mil quince y no vamos a hablar ahora

como ley de bomberos espero que después de corregir el error de este gobierno tengamos una ley de bomberos acorde con las necesidades de la ciudadanía vasca decía también que mostraba nuestra satisfacción porque al final hemos aprobado el proyecto un proyecto que se remite al parlamento como he dicho en septiembre de dos mil catorce

que finalizan el doce de febrero de dos mil quince se designan los miembros de la ponencia el veinticinco de marzo pues bien a pesar de que el gobierno ha acusado sin razón desde nuestro punto de vista a la oposición de los retrasos en la producción legislativa en este caso es el propio grupo que apoya al gobierno el que ralentizó el desarrollo de los trabajos
pues no fue hasta siete meses después unzalu jauna mesedez

por el efecto que ya hemos dicho hemos aprobado pues el noveno proyecto de ley

a la vista está que este gobierno no se ha caracterizado por la producción legislativa si comparamos por ejemplo con la pasada legislatura en el mismo periodo de tiempo se habían aprobado veintidós proyectos de ley

o bien transadas con otros grupos esfuerzo que agradezco a los compañeros y compañera de ponencia y como suele decirse coloquialmente
nunca es tarde si la dicha es buena eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna

ezpata badela euskal industriaren gainean tenemos en este país la desgraciada experiencia histórica de lo que supone

y las consecuencias que eso tiene en convirtiéndose en desindustrialización

económico y social como vivimos en los años setenta y en los ochenta la industria vasca ha sufrido un fuerte proceso estructural entre el año dos mil siete y el año dos mil trece con la pérdida

puestos de trabajo en euskal herria y aunque es cierto que los dos últimos años estamos asistiendo a una mejora

coyuntural y décimos esto no por capricho ni por negar la evidencia de ciertos datos sino por entender que esa mejora viene fundamentalmente ligada a una serie de factores de carácter externo que básicamente son conocidos como los planes de estímulo la depreciación del euro que mejora la competitividad o la bajada de los precios del petróleo

persisten porque no se ha implementado una política de reformas precisamente de carácter estructural y entre los muchos problemas

de hablar aquí en otros momentos hay uno que tiene un carácter central un problema que es con mayúsculas el problema y es como decíamos antes el atraso tecnológico

o de una empresa con una bajo nivel tecnológico es hablar de un sector industrial o de una empresa de riesgo y tenemos que ser plenamente conscientes de ello y por tanto cabe preguntarse con total legitimidad es casi nuestra obligación preguntarnos qué desempeño estamos haciendo en esta cuestión

estamos mejorando en la inversión en tecnología hay un indicador

que hace una economía en el desarrollo tecnológico un indicador que muchas veces nos dice más sobre la economía y sobre la sociedad de un país y sobre las prioridades políticas

del producto interior bruto y es precisamente la relación entre el producto interior bruto y el dinero que se invierte en investigación desarrollo e innovación

o la evolución del propio producto interior bruto nos dicen cómo y dónde está una economía en un momento dado la inversión que hace una sociedad y una economía

nos dice cómo y dónde va a estar esa economía en el plazo de cinco y diez años por tanto consideramos que es un indicador crucial la ratio

el producto interior bruto de una economía el porcentaje de ese producto interior bruto que se dedica a investigación desarrollo e innovación cuál es la realidad de nuestro país cuál es la realidad de nuestra sociedad cuál es la realidad de nuestra economía en relación a la inversión a esta ratio

los resultados y las consecuencias no pueden ser nada alentadoras en el año dos mil quince

provisional los de los años anteriores están ya consolidados por el eustat pero el año dos mil quince

el uno coma noventa por ciento del pib en investigación desarrollo e innovación

uno coma noventa la media europea de los veintiocho es decir incluyendo los países

estamos por debajo de la media europea pero además hay otro dato también preocupante

opuestas mientras en europa está creciendo de manera ininterrumpida en los últimos años la cantidad de producto interior bruto que se dedica a investigación y desarrollo en la comunidad autónoma vasca

tres años consecutivos de descensos y esto tenía que ser una noticia

como prioridad absoluta no solo del gobierno sino del país en el año dos mil doce se invertía en esta cuestión el dos coma seis por ciento del producto interior bruto

en dos mil catorce un uno coma noventa y tres y en dos mil quince el ya mencionado

como es sabido y casi por intuición podría llegarse a esta conclusión los países que más invierten

finlandia y dinamarca alemania también evidentemente se acerca

como japón estados unidos o corea del sur encabezan

dónde estamos en situación relativa en el contexto de las naciones y de los estados en ese contexto internacional pues tenemos que concluir

el uno coma noventa y tres por ciento que se invirtió en la comunidad autónoma vasca en investigación y desarrollo está más cerca del uno coma veinte que se invirtió en españa que del dos coma ochenta y cuatro que se invirtió en alemania en ciencia en investigación

estamos más cerca de españa que de alemania y hay un dato

pero quizá si sorprenda saber que china también nos ha adelantado un país que se supone que solo compite con mano de obra barata

resulta que invierte en innovar en tratar de innovar en tratar de dar un vuelco a su sistema productivo más que la comunidad autónoma vasca un uno coma noventa y ocho por ciento

que supone compararnos con los países del contexto internacional podemos hacer otro ejercicio que todavía más interesante más instructivo y además más preocupante que es compararnos con las regiones europeas que por su naturaleza y su tamaño tienen unas mayores similitudes en cuanto a su estructura productiva con la nuestra esas regiones que en la terminología europea se denomina regiones dos nos vuelven a poner ante una realidad que desde luego no es ni mucho menos la que desde determinadas instancias se vende

con los países con los estados salimos perdiendo en comparación con las regiones industrializadas y tecnológicamente avanzadas realmente los resultados

humillantes para aquellos que pretenden ser el ombligo del mundo hay treinta y ocho regiones europeas

que superan el tres por ciento de inversión en investigación y desarrollo treinta y ocho regiones entre las cuales nuestra comunidad autónoma no se encuentra de doscientos setenta y seis

nos encontramos aproximadamente en el puesto cien es decir un puesto absolutamente mediocre stuttgart baden wurttemberg istria o brabante superan el cuatro por ciento de inversión

estamos por debajo de la mitad de lo que invierten las regiones avanzadas por tanto

invertimos poco y estamos bajando en la inversión hay un objetivo que es el que traemos aquí con la propuesta de hoy con la moción de hoy llegar a alcanzar en el año dos mil veinte el tres por ciento de producto interior bruto invertido en acciones de investigación desarrollo e innovación por qué el tres por ciento no es una cifra fetiche

es un objetivo que la propia unión europea establecía en su estrategia europea dos mil veinte para conseguir como media en la unión y es un objetivo al que estamos muy lejos de llegar

pero del cual a día de hoy y con las actuales políticas estamos muy lejos de llegar tenemos un instrumento en este país un instrumento relativamente nuevo como es el en plan de ciencia tecnología e innovación en el cual se fijan unos objetivos

de especialización en consonancia con la estrategia ris tres se establecen mecanismos de evaluación y también una serie de previsiones de gasto

en su modelo de gobernanza porque consideramos que tiene carencias importantes pero no vamos a hacer una enmienda a la totalidad hoy y nos vamos a centrar en un capítulo que es el relacionado con la moción que nosotros presentábamos que es el del gasto pues bien el pcti no contempla ni siquiera como objetivo

es decir no es que no vayamos a conseguir llegar al tres por ciento

no no es que aun saliendo bien aun activando todas las inversiones que se contemplan en ese plan estaríamos muy lejos de ese tres por ciento porque el plan ni se lo plantea como

nos parece algo bastante grave el plan contempla para el año dos mil veinte que se llegue a una inversión total público privada de mil novecientos nueve millónes de euros hemos realizado tres simulaciones o tres cálculos distintos entendiendo

de crecimiento del producto interior bruto de aquí al dos mil veinte

evidentemente optimista del cuatro por ciento en el caso de que se cumpliera

la cantidad designada en el pcti para investigación y desarrollo llegaría al dos coma cincuenta y nueve por ciento del pib en el caso de que se creciera al tres por ciento

y en el caso de que el crecimiento fuera al cuatro por ciento al dos coma cuarenta y tres es decir en el mejor de los casos

a mitad de camino del objetivo del tres por ciento por tanto creemos que tenemos que decir con toda claridad que en este apartado del gasto

antes de empezar porque ni siquiera formula de forma adecuada y ambiciosa los objetivos que como país debemos exigirnos a nosotros y a nosotras mismas además hay otros problemas en este pcti porque esta realiza las responsabilidades es decir sitúa la mayor carga de incremento de inversión

descarga el peso del incremento de la inversión tanto en instituciones ajenas al país como en la propia empresa privada y si por tanto puede estar sujeto a discusión

con este ámbito evidentemente también puede haber una exigencia y también puede

pero lo que no puede determinarse única y exclusivamente por una decisión política del gobierno vasco es lo que van a invertir las empresas y lo que van a invertir

y por tanto entendemos que aquí hace falta un modelo distinto no solo

sino a integrar políticas en la cual esos agentes llamados a realizar una mayor inversión sean evidentemente motivados y se compruebe que evidentemente cumplan con sus objetivos porque entre otras cosas podemos decir que este último año las empresas

las empresas particulares sobre la cual el pcti deposita la carga del incremento de la inversión

mal vamos si aquellos que están llamados a ser protagonistas de la inversión

habrá que marcar no solo objetivos de gasto sino también habrá que crear una nueva gobernanza de este pcti

y de arrastrar a esos sectores a realizar los gastos que son imprescindibles además la institución que menos crecimiento en la inversión en esta partida se auto impone es el propio gobierno vasco que como decía descarga en otras instituciones

a tener una actitud pedagógica de liderazgo tractora

por tanto hemos empezado mal con este pcti pero quedan cinco años para que

el año dos mil veinte hay tiempo para un cambio de rumbo y tenemos que plantearnos esta cuestión como un reto de país un reto que implique a toda la sociedad a sus agentes sociales sindicales de empresa de universidades y centros tecnológicos y de investigación proponemos a través de esta moción una reevaluación a fondo de los mecanismos y objetivos del pcti

se pueda corregir la dirección y emprender el rumbo en la dirección adecuada porque el rumbo actual podemos constatar que no es que no nos lleve a los objetivos sino que ni siquiera se plantea

una enmienda a la totalidad planteamos una propuesta incluyente en la cual se pueden sentir reflejados yo creo todos los grupos de esta cámara no hay letra pequeña

y creo que este objetivo al menos a nivel teórico es compartido por todos y todas aquí por tanto vamos a dar un cambio de rumbo vamos a dar un paso en la dirección adecuada tenemos en el estado español dos ejemplos uno positivo y uno negativo para que no digan que solo mencionamos españa para criticar el positivo sería el pacto de toledo el negativo la situación de la educación el pacto de toledo sobre las pensiones sin entrar en los contenidos ha supuesto un blindaje al que todos los grupos políticos se ataban
estableciendo así objetivos compartidos y unas amaitzen joan casanova jauna

bai y el mal ejemplo es la situación de la educación en el estado español

arrambla con todo lo anterior y vuelve a partir de cero sin consenso y sin acuerdo yo voy aquí hoy a proponerles a ustedes un pacto por el tres por ciento pero a pesar de que ese dígito se haya hecho famoso por otros pactos inconfesables

ni para robar es un pacto para sembrar no es un tres por ciento para enriquecer deshonestamente a una minoría sino que es un tres por ciento para enriquecer honradamente a toda la sociedad

como país con todos los agentes y con todos los grupos y creemos que es una propuesta abierta

lamento la no presencia de la consejera de desarrollo económico y competitividad

que no solo está en nuestras bocas sino también fuera en la calle la moción que se nos presenta hoy por parte de bildu

nos da una oportunidad a todos para plantearnos el inicio al menos el inicio de un debate sobre la crisis que afecta

y las perspectivas de futuro no somos los únicos preocupados por la situación

porque como se ha comentado y además lo conocen todos ustedes

en bilbao una manifestación unitaria sí unitaria por parte de todas las organizaciones sindicales vascas reivindicando gure industriaren

real esta preocupación no está basada en especulaciones sino que desgraciadamente en datos en la constante pérdida de puestos de trabajo en nuestra industria y en el peso económico

en el conjunto de nuestra economía porque nos encontramos sin duda alguna

para que sea verdadera la salida de la crisis que solo será constatable cuando nuestros jóvenes

y el resto de los parados y paradas tengan opciones de trabajar en empleos de calidad en empleos dignos y para ello

con datos reales vemos que el producto interior bruto cayó un cinco coma ocho por ciento entre dos mil ocho y dos mil catorce en nuestra comunidad

un seis por ciento en españa la diferencia por lo tanto no se aprecia en este dato sino en las diferencias en el valor añadido bruto de las diferentes ramas de actividad así el valor añadido bruto se ha comportado peor

y en información y comunicaciones lo contrario ha ocurrido

cuyo valor añadido bruto se redujo en un nueve coma ocho por ciento en el mismo periodo

y si seguimos planteando que nuestra economía va a mejor

es que todavía contamos con una industria manufacturera de un valor total

un veintitrés coma cuarenta y siete al finalizar el año dos mil catorce eso sí habiendo perdido peso desde el dos mil ocho en dos puntos el menor paro

lógicamente lo que llamamos mejor comportamiento de la economía vasca

sobre las exportaciones ya que el crecimiento de las mismas es justo la mitad de lo que ha crecido españa en sus exportaciones como ejemplo de nuestra debilidad es que el año dos mil quince se sigue comportando así se sigue comportando así ya que el tercer trimestre del año pasado la tasa interanual de las exportaciones creció por ciento en euskadi frente a un cinco coma seis por ciento en españa

al respecto pero he querido dejar datos que nos ilustren para analizar el presente para construir el futuro inmediato tenemos menos paro eso es verdad pero con los datos de la epa la población ocupada en el tercer trimestre de dos mil quince

del dos mil siete mientras en españa la caída en ese periodo de población ocupada es del doce coma nueve por ciento por lo tanto

por el menor impacto de la crisis sino también por la menor tasa de actividad de nuestra comunidad

al proceso de envejecimiento y menor peso de la población extranjera

que nos sitúe señalar que el crecimiento previsto es menor que el de españa para los próximos años y por lo tanto se ampliará el retraso de la recuperación económica y para ello mejor que les vaya bien a españa y a europa

aunque el dibujo realizado tiene el objetivo de situar precisamente a lo que nos hace fuertes es decir a nuestra industria en una senda diferente a lo que venimos sufriendo

están ahí y sé que incertidumbre es una palabra suave para definir

los vecinos los pueblos y las comarcas afectadas de esto ya hablaremos en el punto siguiente nuestra industria por lo tanto se encuentra zarandeada y se lucha por su salvación

desde las universidades también coinciden en algo fundamental la necesidad de aumentar el nivel tecnológico

y la actividad innovadora de nuestras empresas mejorando la eficiencia de las políticas de innovación

para que nuestras empresas y por ende nuestros empleos subsistan y crezcan al calor

y por si ello es necesario que hoy votemos con un sí y por ello es necesario que hoy votemos con un sí rotundo al crecimiento de las partidas

las transferencias de tecnologías entre sectores investigar nuevas tecnologías de producción para consumir menos recursos y consecuentemente reducir las emisiones de ce o dos lograr

que se fabrican con el acero todo esto es lo que hay que hacer para actuar ante los retos de la competitividad del sector siderúrgico además de otras medidas tecnológicas de producción y esto requiere inversiones también desde el gobierno porque son cuestiones del gobierno y que el gobierno apunta

remitido este uno de marzo del dos mil dieciséis pues eso

legebiltzarkideok voten a favor de lo que hemos transado porque va de esto

a otras regiones no solo de españa sino de otras muchas en europa y es que nuestra industria nuestras empresas requieren inversiones

tal como el gobierno reconoce está la consejera ustedes

son fundamentales para el progreso de un país por eso recortar la inversión en este campo no es una medida de austeridad

y un mal negocio y ustedes desde el gobierno lo han hecho su gobierno lo ha hecho los datos no engañan a pesar de la crisis en euskadi

lo hizo el gobierno socialista hasta el punto de que en dos mil diez el gasto alcanzó un dos coma uno por ciento del pib vasco

por vez primera la media de la ue y el dos coma seis en el ejercicio del dos mil doce qué ha pasado desde entonces

en dos mil trece primer año de gestión de su gobierno el gasto

disminuyó el cuatro coma uno por ciento volviendo a situarse en el uno coma noventa y nueve según datos del eustat y en dos mil catorce cayó de nuevo

que mientras tanto los demás países de la ue nuestros competidores siguen avanzando ya estamos a medio punto por debajo de la media europea

porque resulta que esta caída se debe principalmente a la reducción de la inversión por parte del gobierno vasco y no se quejarán de la falta de

ha sido uno de los focos de los acuerdos presupuestarios que hemos cerrado los socialistas con el gobierno e impulsamos hace un año en esta cámara

los recursos públicos destinados a esta materia pero de poco sirve todo esto si el gobierno y el departamento concretamente de economía no solo van en dirección contraria sino que tampoco gastan el recortado presupuesto que destinan

que tenía a su disposición se han dejado de gastar nada menos que ciento treinta millónes de euros el veintisiete por ciento de su presupuesto el año anterior noventa y seis coma nueve millónes el diecinueve por ciento

cincuenta coma cinco millónes a programas de tecnología trece millónes

al fondo de innovación cómo vamos a sacar a la economía vasca de su parón si no se utilizan

disponibles para impulsarla cómo vamos a competir con alemania con suecia

hasta aburrir a las personas que se habían invertido más de cuatrocientos millónes de euros en ciencia y tecnología

no se lo vuelvo a explicar se lo estaba dirigiendo al lehendakari que en este momento no está

un reconocimiento internacional pero a la baja no nos precaricen la vida es una frase de unai sordo secretario general de comisiones obreras de euskadi y con estas

reflexionando urgentemente sobre la política de innovación adoptada por el gobierno y las diputaciones reconozcamos su poca capacidad para promover nuevos sectores y elevar el nivel tecnológico de nuestra industria por ello necesitamos más inversión

señor azkue sabe por qué no está la señora consejera hoy aquí en este pleno pudiendo escuchar los debates en los que estamos porque este era el punto número seis

ahora mismo ella con su equipo con el comité de empresa de

hoy aquí pero tenga claro que representantes de su departamento sí que están presentes en este debate y escuchando a todos los representantes de los grupos parlamentarios

sólido y con futuro sin autocomplacencias cómo no pues debe seguir adaptándose a una situación económica mundial que a veces se muestra frágil

decía que en determinados sectores y problemáticas como puede ser la del acero estamos comprobando lo que significa no contar en el estado con una interlocución institucional eficiente para ayudar a nuestras empresas ante el regulador europeo un motivo más para pedir nuestra voz propia en europa siendo

la del sector del acero en euskadi hay otros muchos sectores y todos ellos apuestan por la innovación por la investigación y por el desarrollo de productos y servicios para adaptarse

y lo hacen en una estrategia común con instituciones universidades y otros tantos agentes antes de hablar de las cifras de inversión necesaria que plantea

hoy de eh bildu sí que me gustaría referirme al camino

el grupo proponente y viendo lo que han firmado entre el partido socialista y eh bildu porque en el camino de la innovación la investigación y el desarrollo llevamos con un gran camino andado y acompañado de los agentes económicos educativos etcétera tenemos en marcha un plan de ciencia tecnología e innovación

de ciencia y tecnología con todos los agentes implicados para que eh bildu en una estrategia habitual por parte de ellos y en este año dos mil dieciséis solicite al gobierno un plan a desarrollar en los próximos cinco años como si no hubiese

andado la verdad es que nos sorprende mucho no nos parece de recibo señor casanova recuerdo el año pasado por estas mismas fechas también tener debate solicitando la señora celaá más aportación al plan y en la misma línea se le pudo responder también pero lo que diferencia el debate del año pasado

el grupo de eh bildu piden un tres por ciento del pib antes de cinco años en investigación y desarrollo

ya lo hemos conseguido exactamente en un tres coma siete por ciento

aquí lo dice y no me lo estoy inventando lo dicen los datos del eustat un tres coma siete por ciento en el año dos mil catorce respecto al pib eficiencia de este gobierno o lo pondrán en duda la eficiencia de este gobierno

en guerra de números pero yo como ustedes han facilitado los suyos voy a facilitar

del eustat estos datos tienen que ver con la literalidad de la moción inicial de eh bildu y de ahí puede venir el descuadre

según la encuesta de innovación tecnológica del eustat otra cosa

en la que estamos en el uno coma noventa y tres por ciento

a la de países de alta innovación europeos por cierto en cualquier caso veo que compartimos eso sí es cierto el hecho de apostar por pedirle al gobierno esfuerzos en este sentido se lo dijimos a la señora celaá hace un año si se puede incrementar la partida en el pcti de aquí

en cuanto a la economía así lo permita y se está haciendo además incrementando las partidas según el calendario previsto en dicho plan miren nuestra estrategia como ya lo hemos trasladado en nuestra enmienda de totalidad es el pcti euskadi dos mil veinte una estrategia consensuada y con un plan de financiación aprobado hasta el año dos mil veinte

nos encontramos que la convocatoria de dos mil catorce fue de ciento veinticuatro millónes de euros en dos mil quince

millónes de euros y la previsión para este año dos mil dieciséis señala que será de ciento cuarenta y seis millónes de euros hemos incrementado las partidas en un ocho coma cuarenta y nueve

y en otro ocho coma ochenta y nueve por ciento que se incrementarán en este año dos mil dieciséis por otra parte la inversión hay que olvidar que tiene que ser pública y sobre todo

que en la medida de lo posible también tienen que ir aumentando las instituciones públicas por si solas no pueden hacerlo todo

la cercanía el mercado y muy importante la colaboración entre agentes de la red vasca de ciencia tecnología e innovación y las propias empresas como el gobierno

que nos ofrezca no solo los resultados de los programas de apoyo sino del impacto de los mismos el cuánto pero también muy importante el cómo se hacen las cosas lo señalaba también la propia consejera tapia podemos afirmar que el sistema vasco de ciencia tecnología e innovación goza de una muy buena salud dada los condicionantes del contexto económico actual afirmación medida

que ha crecido ligeramente desde el dos mil catorce habiéndose incrementado de forma interrumpida en los últimos años segundo la posición de euskadi en el

de innovación de países y regiones que no ha parado de mejorar desde el año dos mil siete y a unas tasas de crecimiento por encima de la media europea gracias a ello desde el año dos mil catorce euskadi forma parte de grupo de países de alta innovación

del grupo de regiones de alta innovación punto número tres la producción científica en euskadi que superó por vez primera las cinco mil publicaciones en el año dos mil catorce aumentando la colaboración

según el informe de ikerbasque y cuarto la participación y financiación obtenida por euskadi en el programa marco europeo dos mil veinte que en el año dos mil catorce

en euskadi estamos apostando siguiendo el modelo europeo ris tres por una estrategia de especialización inteligente y mejora de la eficiencia del sistema

la fabricación avanzada la energía y la biosalud para ello nuestra hoja de ruta pasa necesariamente por incrementar la inversión

las empresas y los agentes de investigación y para ello estamos revisando nuestros programas de apoyo a la investigación e innovación en línea con los principios establecidos

y mejores resultados como resultado de toda esta revisión de nuestros instrumentos durante este año durante el pasado año dos mil quince y este año dos mil dieciséis

al ocho por ciento se incrementa por tanto la aportación a programas de innovación se evalúa su funcionamiento se puede ajustar como no la financiación

en referencia a las posibilidades que cada ejercicio permita pero no lo que no podemos aceptar es que se plantee que haya un nuevo pacto

de cero los pactos siempre han sido y siempre serán bienvenidos pero señores de eh bildu señores del partido socialista estamos en la parte de ejecución no de elaboración de ningún plan por lo tanto mejoremos sobre lo ya andando porque no tiene

gracias presidenta buenos días de nuevo señor consejero agradezco mucho su presencia porque por lo menos hay alguien del gobierno a quien este asunto

nos ha dicho que por el cambio del orden del día la consejera no ha podido asistir pero echo de menos al lehendakari que no está porque yo creo que este es un problema de suficiente calado de suficiente importancia

aunque parece que no todos tenemos la misma opinión lo cierto es que visto el debate del día dieciocho el señor casanova no dudaba yo que iba a tener usted que presentar

ella simplemente le respondía con que

usted no se lo ha estudiado usted no conoce usted no sabe argumentos que casi más que para contraponer sus planteamientos

pero descalificaciones al fin y al cabo y le aseguro que todos esperábamos su moción

el por qué finalizaba ella su intervención diciendo que somos un ejemplo para europa y que toda europa nos mira

ahora y nos toman como ejemplo yo no sé no acabo de comprender ese argumento

no sé si es que consideramos que europa es nuestro enemigo que son nuestros competidores directos y entonces vendemos que lo estamos haciendo muy bien para que nos

y se estrellen ellos posteriormente y nosotros nos quedemos con los mercados

y resulta que las cosas no van tan bien y toman las decisiones que toman como nos está ocurriendo

podemos hablar de la industria del tubo en álava especialmente en el valle de ayala

muy bien pero que se marchan debe ser que las campañas de propaganda no llegan hasta ellos

yo les compro la idea por supuesto que nos interesa sustentar nuestro modelo industrial dar importancia impulso

desde todos los aspectos y ese límite del tres por ciento que parece que ya lo hemos superado quizá hay que subirlo porque no es efectivo o quizá el dato

es interpretable eso se lo compramos estamos todos de acuerdo el compromiso creo que es unánime los setenta y cinco miembros de la cámara estarán de acuerdo

de las dos propuestas que nos hacen pero es que el segundo a mí me parece del todo increíble tanto el suyo como la propuesta que hace el partido socialista estamos buscando un pacto social un pacto

entre empresas la universidad nuestros investigadores las administraciones y los sindicatos es imposible un pacto con los sindicatos entre que los tiempos que miden o en los que se solicitan que lleve a cabo la moción prácticamente imposibles o del todo imposibles de cumplimiento porque estamos acabando ya la legislatura y abrir nuevos debates va a ser muy complicado

no lo vamos a encontrar en época preelectoral ese pacto social con la representación de los trabajadores es imposible la interlocución no puede ser peor y eso que la consejera nos niega que exista conflictividad laboral nos lo decía el otro día en la comisión debe ser la única que no se ha enterado de los problemas que hay con los sindicatos no hablemos de la función pública vamos a las empresas

producción a otros sitios conseguir ese pacto en un espacio de dos meses me parece imposible y por eso me ha sorprendido tristemente

por el plazo y por intentar que se consiga algo que no es verdad no podemos negar esa conflictividad

muchos problemas respecto a la moción del partido nacionalista vasco pues la verdad es que si vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo y diciendo que qué bien lo estamos haciendo

y otras más que existen que son más desconocidas por el tamaño que tienen

lista de empresas que tomen el mismo camino porque las soluciones que se han planteado aquí no valen no valen porque se ha hecho una política presupuestaria de dibujos animados

se le llaman inejecuciones técnicas creo que decían veinticinco un treinta por ciento del presupuesto en áreas como esta pues a mí me parece que

más bien absoluto desinterés o directamente que han decidido tirar la toalla

punto y les animamos a que puedan modificar el segundo punto de ambas mociones haciendo algo más concreto algo más constructivo algo más veraz porque pretender que este gobierno llegue a un pacto con los sindicatos en el plazo de dos meses nos lo traiga aquí y lo podamos debatir y hagamos un proyecto para que los siguientes gobiernos lo apliquen los próximos años me parece una cuestión

de la consejera verdad que parece que está tan convencida de la bondad absoluta de sus planes y de las realidades de sus planes

cuando evidentemente lo que conocemos no solo son sus planes sino las consecuencias objetivas mensurables en datos de esos planes o de los errores o de las carencias de esos planes y ya que usted ha empezado con esa cierto tono conciliador yo le voy a plantear que si no cree en ese segundo punto por lo menos se abstenga es decir que no sea su falta de fe la que impida que este acuerdo salga adelante porque además independientemente de que las condiciones den

los plazos que nos quedan se pueda materializar este plano

claro y rotundo a la sociedad y un compromiso de esta cámara con este objetivo no sé si conocen ustedes que cuando presenté la moción en parte por falta de experiencia parlamentaria encabezaba el primer punto haciendo una mención a que todos los partidos presentes en la cámara solicitan y desde la mesa se me pidió corregirlo porque decían que eso era una declaración institucional y es cierto que inconscientemente eso es lo que estábamos buscando con esta propuesta una especie de declaración institucional

les emplazo a que no obstaculicen por lo menos a ese nivel veremos hasta dónde llegamos y si no

señora corrales es que su partido y el gobierno que su partido sustenta acepte con total naturalidad que no se van a cumplir unos objetivos marcados por la unión europea

de cumplirlos cuando hablamos de ese tres por ciento y no vamos a entrar en subterfugios con los datos estamos

cuando hablamos de ese tres por ciento estamos hablando de desarrollar un objetivo europeo

que es complejo no es hacer sonar una flauta mientras se pasta como le pasó al asno de la fábula es un objetivo complejo que si no se plantea es imposible no conseguir y ustedes están consolidando

eso en términos económicos y sociales es una muy mala noticia para este país que renuncien a ejercer ese liderazgo en realidad es que ustedes en programas dedicados

que cuando entraron al gobierno están dedicando su último presupuesto ciento cuarenta y siete millónes en programas como gaitek etortek y demás cuando en dos mil doce se gastaron ciento sesenta ese es el balance de su legislatura

con el señor urkullu inaugurando permanentes de factorías con una bata blanca a un ritmo mayor que el de y luego besando niños y demás pero la realidad es la que es

que al principio de su legislatura ustedes han reducido y ese es el balance de sus mil días

que hay personas que cambian o grupos que cambian su voto en función de lo escuchado aquí

quiero creer que existe esa posibilidad voy a hacer un llamamiento a la represión

un pib ciento cincuenta veces mayor invierte

sino en términos relativos qué argumento racional se nos puede dar para no pensar que en un breve plazo de tiempo van a sobrepasarnos tecnológicamente

hay alguien que pueda pensar que si se sigue manteniendo esta distancia incluso incrementando esta distancia entre china y la cav en términos

y que no hay condiciones medioambientales ni sociales que en parte es verdad cuánto nos va a durar

millónes de dólares en el año dos mil doce en investigación y desarrollo en china

y hemos podido llegar a lo largo de este debate a una serie de conclusiones que creo que deberían ser compartidas es especial para nuestra economía la tecnología es crucial para la industria

requerido necesitamos llegar a ese objetivo del tres por ciento

en investigación y desarrollo y para eso es necesario no un plan nuevo sino un pacto social que complemente las carencias

vasco fuera de este debate se ha autoexcluido no planteamos una enmienda a la totalidad solo queremos compensar dos elementos

evidentes fallos en el actual planteamiento por un lado la cuestión presupuestaria porque no se marca los objetivos adecuados y segundo la gobernanza de este plan que está demostrándose incapaz de implicar a terceros agentes no solo al gobierno vasco cuya aportación económica es imprescindible

para implicarles en asumir mayores compromisos eso es lo que les proponíamos y me resultar descorazonador que se queden en el todo va bien

lo que se aprueba en esta cámara vote lo que vote el pnv este gobierno debe de cumplir

prácticamente la explicación es que no que les da igual prácticamente prácticamente digo porque hay algo

de innovación con las mismas cifras que hoy se están planteando aquí por cierto

de aplicación por parte del gobierno pero con las mismas cifras fue aprobado por esta cámara

ejecútenlo hay un tema eso es como la b alta y la b baja no hagamos trucos sobre la primero alta y la primero pequeña

porque esa es la realidad y eso es lo único que nos mueve en relación a que se apruebe entre todos esta moción

porque no se ha dado hace dos años la situación que hoy se sufre en nuestra industria

se está dando ahora y requiere ese esfuerzo y si no no estaremos actuando bien si no vamos a permitir esa reducción

reducción que en ningún caso y esto es lo que quiero recalcar puede ir además acompañada en recortes en lo que todos décimos defender

cuyas cifras he dado de un departamento que tiene que velar precisamente por la consolidación y el futuro de nuestra industria yo creo que estos son lo que hemos querido reflejar y lo expresaba el compañero de eh bildu sin ningún tipo de acritud solicitando la suma porque

que teníamos hace dos años que ahora sí los compromisos los compromisos son los mismos y lo que les pedimos es que se cumplan

he expresado aquí de verdad nos encantaría decir

nos encantaría afirmar ese tema pero acabamos de ver los datos algo tendrá que ver

de lo que se dedica o dedicamos a la investigación y después lo que se produce o lo que se transmite de ella

no sabía hacer barcos hace veinte años teníamos nosotros una industria bien preparada hoy tras muchos años de dedicación

en la construcción naval corea no nos vende solo barcos sino nos vende cómo hacerlos eso es lo que pretendemos con lo que hoy traemos aquí que sigamos siendo punteros en lo que hay que hacer que sigamos teniendo sobre todo lo que hasta ahora siempre hemos tenido

fuerte para mantener de verdad una economía vasca fuerte eskerrik asko

mire señor casanova teníamos dudas de qué le ha motivado traer esta moción si el desconocimiento de la realidad de la inversión en investigación o lo que está es intentando colocar mensajes erróneos en nuestra sociedad entonces no voy a poner en duda su labor como parlamentario porque creo que le dedica

voy a optar por la segunda es decir usted quiere trasladar a nuestra sociedad unos mensajes

en mi primera intervención yo no me estoy inventando los datos el eustat ya dice que en el año dos mil catorce superábamos ese tres por ciento que ustedes dicen

son sus datos contra los míos lo único que quieren es tergiversar la información y trasladar información errónea a nuestra sociedad claro que no renunciamos a ejercer el liderazgo nosotros no décimos que no vayamos a conseguir o que no vayamos a cumplir los objetivos solo décimos

actuaremos con decisión con precisión y con una apuesta importante que es lo que estamos haciendo en los últimos años pero también con realismo

con realismo porque en cuanto a la financiación ya se ha dicho más de una vez que siendo conscientes de la coyuntura y de las posibilidades de aportaciones económicas adicionales al plan las previsiones de crecimiento de nuestra economía marcarán los recursos cómo no que dispongamos para poder hacer crecer esa inversión

en base al cuadro de financiación que va desde este ejercicio hasta el año dos mil veinte luego lo que somos en este gobierno somos realistas y trasladamos a la sociedad una situación real ese es nuestro objetivo

ustedes siguen centrándose en el índice del

dos mil quince por primera vez euskadi se equipara con el grupo de países europeos de alta innovación otra de las demandas que solicitan en su moción también por lo tanto está resuelta y así seguirá departamento y este gobierno vasco la comunidad autónoma de euskadi se sitúa al nivel de los países con alta innovación en dos mil quince según el índice europeo de innovación ius en relación a dos mil catorce mejora ligeramente el valor del indicador datos de eustat

países con alta innovación se encuentran los que logran una puntuación entre el noventa por ciento y el ciento veinte por ciento de la media europea en este caso los países bajos luxemburgo reino unido irlanda bélgica francia austria y eslovenia

se situaría a la altura de este grupo al alcanzar el noventa coma ocho por ciento de la media de la e u veintiocho no me lo invento

del eustat sacados esta misma mañana muchas veces lo que este grupo parlamentario

los grupos aquí presentes no valoran justamente el esfuerzo que realizan las empresas por la

en euskadi de contar con un tejido empresarial que apuesta por la innovación

con hechos muy por encima en este caso de la media europea y hoy hemos podido desayunar con una noticia del periódico el economista que dice euskadi logra que la ue financie doscientos millónes de

ha captado el equivalente al cuarenta y dos por ciento de lo logrado en los siete años anteriores en solo dos años de vigencia del nuevo marco de financiación europeo se ha logrado captar una cifra equivalente al cuarenta y dos por ciento de todo lo captado en los siete

por lo tanto señor casanova señor azkue este país euskadi sigue funcionando con o sin ustedes las empresas apuestan siguen apostado por la investigación con o sin ustedes euskadi

una gran parte de los fondos europeos con o sin ustedes este país señor casanova señor azkue va a salir adelante como lo ha hecho siempre

gracias señora presidenta pues me reitero en los argumentos que he utilizado en el primer turno en esta intervención parece ser que efectivamente y como no ha hecho mención a ello la señora corrales ese pacto social que proponen los grupos de la oposición es imposible porque no ha hecho

también debe ser cierto que cerca del treinta por ciento del presupuesto del departamento de la señora tapia dedicado precisamente al fomento a la creación de nuevas empresas

a fomentar el trabajo y la riqueza de este país no ha sido ejecutado y que debe ser exclusivamente una cuestión técnica porque tampoco me ha contestado a nada de ello insiste en que de esto ya se habló en el dos mil quince

pues si se reitera la petición en este parlamento será porque no se ha hecho nada y porque efectivamente los presupuestos que tenemos en marcha le vuelvo a repetir son presupuestos de dibujos animados muy bonitos pero que en el fondo

para nada yo considero que sería necesario que hicieran un poquito de autocrítica

los empresarios piensan que las cosas no van bien y por eso cierran y se marchan algunos

no a perder a los que ya tenemos los trabajadores no están contentos los sindicatos no están contentos los vemos todos

familiares conocidos y amigos en situaciones muy delicadas debidas la crisis y a que no se han tomado las medidas necesarias

la varita mágica para corregir todos los errores pero desde luego lo que se ha hecho no está bien hecho y si ustedes nos dicen que a pesar de todo eso cumplimos todos los objetivos somos fantásticos y somos el ejemplo de europa debieran ustedes de hacer una campaña de prensa

trasladando a empresas y a trabajadores que las cosas van muy bien y que se han cumplidos todos los objetivos porque ellos no se han enterado

no se ha enterado nuestro crecimiento de empleo no se ha enterado cuéntenlo ustedes hagan más campañas llegan las elecciones a nadie le va a sorprender porque las cosas no salen bien y efectivamente señor casanova esto debiera de ser una declaración institucional pero no lo es no lo es porque yo quiero ser prudente bueno desde mi grupo

porque es imposible que lo cumplan este gobierno no tiene ningún tipo de interlocución social no hablan con los sindicatos no se hablan han dejado de hablarse con lo cual

ningún tipo de plan para debatir en este gobierno

lógicamente hace imposible que esa cuestión cambie porque la autocrítica no existe y las ganas de mejorar tampoco

no vamos a mejorar aunque fuera cierto que todo se ha hecho bien

que todo lo que se haya hecho se haya hecho mal pero podrían

tratar de corregir y tratar de mejorar por eso si aceptan la votación por puntos votaremos a favor del primero y nos abstendremos en el segundo muchas gracias

y no solo son los trabajadores directos los afectados tal como venimos repitiendo en esta cámara sino los eventuales

y a los que les afectan las situaciones de estas crisis en las localidades y sus comarcas hostelería comercio transportistas puertos los gobiernos y el nuestro también deben ser previsores

el gobierno vasco anda tarde y mal en la respuesta que un ejecutivo debe dar ante los problemas que se plantean les ha pillado a contrapié se lo decía al lehendakari lo vuelvo a decir ante todos ustedes qué fácil es gobernar envueltos en la nube del todo va bien aunque haya síntomas de borrasca

es necesario tener estrategias preparadas y no sirve esconderse en la calima

nolakoa den azaltzen da y el gobierno anda tarde y mal porque nadie puede negar

desde hace más de un año y que no se ha actuado ante lo que venía los socialistas defenderemos cualquier esfuerzo que se haga posible para mantener los empleos en el sector del acero pero no queremos ser cómplices en estrategias que aparentan en algo no resuelven nada

sin ofrecer alternativas y mucho de esto hay en los últimos movimientos del gobierno en estas últimas semanas que han sonado más en aparentar que a hacer por nuestra parte hemos pisado

el gobierno y hoy estamos trasladando al gobierno de euskadi ideas para que las tome en serio y en todo lo que esté a su alcance

los socialistas creemos que la agenda vasca hoy debe estar en bruselas

vascos de arcelor los trabajadores vascos de sus empresas auxiliares

la agenda de las familias vascas afectadas en estas comarcas la agenda de la propia vida de los vecinos de estas comarcas no se puede no se debe como le escuchábamos ayer al lehendakari exigir prontitud a los demás que efectivamente deben actuar

los deberes en casa no se puede pretender que la ciudadanía

que aquí somos buenos y que son otros los de fuera los que fallan y también hemos visto en los últimos días de forma sorprendente que otros solo creen que la agenda vasca en estos asuntos hay que llevarla al congreso mientras aquí en esta cámara no nos explican nada no nos proponen nada

cómo el partido que apoya a este gobierno protesta porque en madrid el otro gobierno no haya considerado que sus dudas

y merezcan una respuesta sorprendentemente sí porque aquí fueron el pnv y el pp quienes consideraron que este debate de hoy no es urgente sorprende mucho también que este gobierno asumiera como victoria el que

la ley para la garantía de suministro incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares

hace dos años y pico que nuestro gobierno nos anunció que con esta regulación las empresas iban a ver bajar sus facturas y que eso

está visto que no sino no estaríamos repitiendo aquí fuera que hay que revisar esas tarifas también nos sorprende la mezcla de mensajes variopintos en las declaraciones y titulares que se leen o escuchamos

este gobierno no puede hacer o poco puede hacer a este gobierno tiene un plan de entre estas dos frases pasó un fin de semana

pero después se aclaró que no que al parecer en esto del debate con arcelor estaban ustedes desde septiembre

para articular un plan real tanto para la viabilidad

por la crisis del acero planes de acción de diversificación de inversiones de estudios alternativos que minimicen primero y establezcan después políticas de y modernización y sorprende esta actitud cuando si algo hemos sabido hacer bien en este país ha sido cuando se ha sabido concertar esfuerzos sea en lo que sea en sanidad en educación en política lingüística y en reordenación industrial del país todo eso se hizo sumando

recordamos entonces diseñamos políticas y alternativas para el futuro ahora no este gobierno se está dedicando a gestionar como puede lo que pasa

buscar complicidades porque sí una vez más se lo décimos que hay un problema con el dumping de china

que en madrid necesitamos un gobierno cómplice en la defensa del sector y qué más eta guk zer se lo decía a la consejera ongi etorri tapia en la comparecencia que hemos tenido en el parlamento hace pocos días y lo repito de otra manera aquí de verdad cree

que poco puede hacer porque los socialistas creemos que no que tenemos

este parlamento sin el voto del pnv ya ha acordado que debemos articular protocolos de acompañamiento a los trabajadores de empresas en crisis nos dijeron que no y hoy nos consta no que no hubo una manifestación de una dirigente de eaj diciendo que sí sino que se hace

porque era necesario hacerlo y tal como establece también hoy en su primer punto la enmienda transada porque además de las empresas que hoy están en titulares expreso de nuevo nuestra solidaridad y compromiso a los trabajadores de arcelormittal de zumarraga hay otros

a los próximos meses con incertidumbres y en esas empresas hay trabajadores y trabajadoras que conocen de primera mano cosas que a veces

y porque llevan una experiencia de negociación que hay que poner en valor sin su apoyo sin el apoyo del pnv este parlamento acordó que se hicieran planes de formación específicos a los trabajadores que estuvieran en ere para adaptar sus conocimientos a las novedades y retos

hace casi dos semanas leímos a una cualificada responsable institucional que

como tiene que ser porque qué otra cosa son las políticas activas de empleo los itinerarios profesionales esas funciones que tienen asumidas lanbide

tenga también en sí bastante sinrazón hasta que ustedes

créanse de una vez que tenemos trabajadores y trabajadoras cualificados en estas industrias y que han mostrado su compromiso para adaptarse a las dificultades y sacarlas adelante

crean ustedes en los trabajadores que no lo hacen al menos con la convicción necesaria y añadimos a esos mandatos de los que ustedes se han desentendido los que planteamos hoy porque desde el grupo socialista

en los esfuerzos sinceros y serios no en actos de propaganda somos los que hemos favorecido los presupuestos y les décimos que estamos dispuestos

las partidas que fueran necesarias para hacer más eficaz lo que acordamos hace unos meses nosotros facilitamos partidas

y decir cuánto presupuestamos aunque eso no se corresponda con lo que se ejecuta como se ha demostrado en el último ejercicio y no deja de llamarnos la atención que sabían ustedes desde septiembre

de los supuestos planes que habrían planteado en el proyecto de cuentas pues bien

que si hay una propuesta seria acordada con los representantes de los trabajadores y trabajadoras

y esto lo manifestó la consejera reordenemos si es necesario las partidas presupuestarias oportunas que salven al sector

y sabiendo que las amenazas van a ser permanentes en este mercado globalizado en dos meses presenten a este parlamento un plan acordado con diputaciones ayuntamientos afectados y representantes de los trabajadores y presentemos planes de dinamización e impulso económico y social

de las empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo que son prácticamente todas las relacionadas con el acero les conminamos que cuanto antes y con el mapa de plantas en la mano

de garantías de futuro y sí también les pedimos que hurguen

de ayudas europeas como ya les hemos pedido sin tener nuevas noticias y que corrijan su propio acuerdo sobre las tarifas eléctricas

que puedan aparecer tener altura de miras no es mirar más lejos a pekín bruselas o madrid tener altura de miras es ver quiénes están más cerca a los centenares de familias en zumárraga de sestao o de amurrio que temen una espantada y un declive general con esta enmienda transada ponemos nuestra disposición a un trabajo que nos compromete a todos trabajen ustedes con rapidez para evitar

y para construir un futuro alternativo siempre y los demás estamos dispuestos a luchar con o sin ustedes aunque preferimos que no se use más el con o sin ustedes y que sea conjuntamente como es el caso de hoy el que aportemos soluciones
a la crisis que vivimos eskerrik asko eskerrik asko

en el oráculo de delfos donde hay una piedra que llaman el ónfalos que significa el ombligo

situó el centro del mundo sé que hay algunos o algunas que piensan que el ónfalos

en un edificio del barrio de abando concretamente en sabin etxea pero el mundo es más amplio y cabemos

hay muchas oportunidades para discrepar entre los grupos que estamos presentes en esta cámara pero también hay oportunidades para acordar y a veces hay oportunidades para acordar algunos aspectos aunque se discrepe en otros y yo efectivamente

con ustedes y con ustedes porque creo que a veces la colaboración es más eficaz que la disputa estéril

porque creo que tenemos suficientes diferencias en cuanto a modelo de país de sociedad y de concebir la política como para tener discusión para rato

creo que hay que saber cuáles son los momentos en los que hay que centrarse en ese debate y cuáles son los momentos en los que hay que centrarse en la búsqueda de los acuerdos y yo creo que este era precisamente uno de esos segundos momentos uno de los momentos en que tenemos que poner

un mensaje de unidad y un mensaje de respaldo a las personas a las empresas y a los sectores que lo están pasando mal concretamente en el ámbito del acero pero una solidaridad que desde esta cámara o por lo menos desde esta tribuna hago extensiva

lo están pasando mal en estos momentos decía que es tiempo para el acuerdo lo que no significa que no vaya a

en mi intervención críticas dirigidas tanto al gobierno vasco

no tienen que servir y desde luego a nuestro grupo no le han supuesto un obstáculo a la hora de acordar un acuerdo

es correcto adecuado y creemos que es el acuerdo que este momento y esta situación exigía al gobierno vasco tenemos cosas que reprocharles en la gestión de esta crisis creemos que ha andado tarde tarde y mal en algunos aspectos

los médicos cobraban cuando los pacientes estaban sanos y cuando enfermaban dejaban de cobrar al revés de lo que hacemos aquí y es que la función de un buen médico tiene en su fondo esta cuestión la función de un buen médico debería ser fundamentalmente prevenir efectivamente en esta vida hay cosas que son difícilmente previsibles pero otras por suerte o por desgracia

y lo que está pasando con el sector del acero vasco no puede decirse que haya sido una crisis súbita y repentina sabemos que este gobierno tenía perfecta constancia no solo del panorama global de este sector como otros que ya mencionamos

por crisis globales sino que tenía también perfecto conocimiento de la situación de las dos plantas que han sido las primeras en caer en esta crisis tanto la acb

sabemos que era consciente de esa situación y sabemos

y ahora llega ir deprisa y corriendo cuando ya tenemos los ere o las amenazas de cierre encima de la mesa actuando con improvisación y muchas veces

llevando a cabo maniobras de mal gusto como la filtración de la noticia de que estaba cerrado el acuerdo para la reapertura de la acb justo el mismo día

una filtración de un acuerdo que desgraciadamente y nos gustaría decir lo contrario pero que desgraciadamente aún no está cerrado y hacer ese tipo de juegos nos parece jugar con los sentimientos de la gente también a arcelor tenemos que reprocharle cosas

que como decía el otro día un dirigente del partido nacionalista vasco haya actuado como una multinacional sin corazón

efectivamente es un auténtico pleonasmo una redundancia

solo tiene bolsillo y efectivamente hay que tratarlas con cuidado hay que tratarlas como cuando se da de comer a una fiera porque a veces

encubierto de concentración de la producción en aquellas factorías que ofrecen una mayor rentabilidad a corto plazo y que eso es precisamente lo que se encuentra detrás de la situación que se está viviendo tanto en sestao como en zumárraga

a estas plantas después de una mala gestión después de una falta de compromiso después de una ingeniería contable en algunos casos para intentar agrandar las pérdidas

a la opinión pública las decisiones de cierre y después de no dar de trabajo adecuada pero como decía las críticas no tienen que monopolizar la actual intervención sobre todo porque tenemos entre manos un acuerdo en el que efectivamente hemos hecho todos y todas los que lo suscribimos

darle un carácter integrador y dar prioridad a mandar un mensaje a los trabajadores y trabajadoras como decía y al conjunto de la sociedad de que se pueden hacer cosas y de que hemos elaborado un listado

que pueden resultar en estos momentos y ante una crisis que está provocando graves afecciones que pueden resultar útiles para tratar de revertirla pero sobre todo y como decía al principio estaría bien tener la filosofía de la prevención del médico chino que cobra porque sus pacientes no se pongan enfermos y no ir detrás pero decía que existen esas medidas y esas medidas son oportunas y son medidas que creo que cabe resaltar y poner en valor en primer lugar y lógicamente como no puede ser de otra manera

hay que quitarse la chaqueta no solo y vuelvo a hablar no tengo ninguna obsesión pero vuelvo a hablar

no solo para salir más majo en los vídeos sino para arremangarse y trabajar de verdad a pie del terreno y hay que tratar de salvar la fábrica de acb

porque se pueden y se deben hacer cosas y efectivamente y esto es un punto que le damos gran importancia si eso requiere modificaciones en el ámbito

creemos que hay que estar dispuestos a ello también nos parece muy importante el segundo punto de esta moción porque contempla tres cuestiones importantes primero

son importantes incluir y yo creo quizás no estoy completamente informado pero creo que por primera vez se habla de la perspectiva del desarrollo local en una

a trabajar y a desarrollar y en tercer lugar se pone en valor la ponencia parlamentaria que se está desarrollando para el estudio de la situación socioeconómica de ezkerraldea zona minera y oarsoaldea creo que esos elementos son importantes porque nos dan

aquí en otros momentos las cosas hay que hacerlas de forma colaborativa integrando

de los proyectos a todos los agentes que estén implicados y no se puede hacer única y exclusivamente de arriba a abajo y por tanto creemos que este segundo punto nos da unas claves muy interesantes también en tercer lugar reclamamos que toda empresa que sea objeto

establezca una serie de compromisos de vinculación con el empleo y el territorio no se pueden dar y a pesar de que entendemos que en situaciones de crisis todos somos propensos a tratar de ayudar

factoría no se cierre pero efectivamente siempre tiene que existir la contraprestación y el contrapeso

se comprometa con el mantenimiento del empleo en el territorio y como decíamos

nos ha generado ya suficientes dudas como para no fiarnos de ellos en absoluto y exigir que cualquier ayuda y cualquier trabajo lleve como contrapartida por su parte este mencionado compromiso hablamos también del acero reciclado y es un concepto que desgraciadamente es poco conocido pero que deberíamos utilizar esta crisis

como palanca para poner en valor un producto que se fabrica aquí en euskal herria se fabrica en la factoría de sestao que es un producto que convierte residuos en acero es decir que hace el ciclo de reciclado precisamente y utiliza para ello un menor consumo de recursos y de energía y creemos que es necesario bonificar este tipo de prácticas creemos que es un elemento desconocido

hasta instancias estatales europeas para poner en valor el uso de este producto que es el que se produce

sestao entendemos también que es importante garantizar la presencia del gobierno vasco en todos los foros y más entendiendo que a pesar de las distancias y de las críticas pero entendiendo que es a quien le corresponde

entendiendo el mutis por el foro la ausencia dolorosa que por parte del ministro del ramo en el estado español se ha producido al respecto pensábamos

de la crisis del acero han tenido reflejos incluso en este ministerio descabezado para pedir que se anule la emisión de etb en nafarroa

y muy seria en el ámbito del acero y ya voy concluyendo mencionando los últimos puntos como

para fortalecer el desarrollo económico y ayudar a las empresas e industrias del país

el sobrecosto eléctrico para las empresas de uso intensivo de esta energía y finalmente

de dumping se suele mencionar la cuestión de china pero prácticas de dumping en general y competencia desleal que pueden existir amaitzeko eskertu nahi dut puntu honetan eta aurrekoan

izan badira son todas ellas palabras de la consejera de desarrollo económico y competitividad del gobierno vasco la pasada semana en comisión parlamentaria bastaría con lo señalado para mostrar el compromiso que el gobierno vasco

no obstante y para abarcar la totalidad de lo expuesto en esta pnl merece la pena enmarcar brevemente el asunto

produce el cincuenta por ciento del acero de horno eléctrico del estado y el diez por ciento de la unión europea lo que le sitúa como tercer productor

la facturación supera los cuatro mil novecientos millónes de euros

simboliza mucho el peso de este sector en este país hoy las acerías vascas de un modo similar a las europeas afrontan un escenario enormemente complicado

la crisis económica del dos mil ocho ya dejó el sector del acero vasco debilitado pero la competencia de bajos precios e importaciones baratas está provocando una crisis en el sector de enorme relevancia según eurofer

en el sector del acero desde el dos mil ocho sobre todo debido al desplome de precios por exceso de capacidad a la reducción de la demanda y a una

es efectivamente la economía china y en parte la rusa y su sobrecapacidad el ariete que está intentando desmontar el sector europeo y el vasco al que deberíamos añadir evidentemente las coyunturas de

si a esas coyunturas que ya de por sí causan daño se les añade el problema estructural

el daño incrementa enormemente su magnitud no obstante estos problemas se podría afirmar que si bien

aunque se vea afectada por la desaceleración mundial el sector del acero sí tiene serios problemas

hay personas que debido a ello lo están pasando mal y que por tanto pasan a ser primera preocupación del gobierno vasco y del grupo parlamentario que hoy aquí estoy representando

lo que no significa que ya se estén haciendo cosas a pesar de lo que se diga

fundamentalmente por el dumping chino y por otra la concreción del problema de alguna planta

que aparte de los problemas generales del sector acusa la caída en picado de su mercado natural que no es otro que el de la construcción a lo que en este caso se une la falta de decisiones e inversiones por parte de la empresa

independientemente de que hace tiempo ya se les venía ayudando

las últimas semanas se han venido abordando las coyunturas concretas con una cantidad relevante de gestiones

que sus señorías además ya conocen baste como ejemplo que si el día veintiuno de enero acb de sestao paralizó su actividad el veintisiete de enero de ese mismo mes el lehendakari junto a la consejera arantxa tapia se reunieron en bruselas tanto con el comisario de energía como con el jefe de gabinete de la comisaria de comercio para abordar

y ya el ocho de febrero se constituyó la mesa del acero en la que empresas sindicatos y gobierno analizan la afección de los costes energéticos en las acerías vascas

afectadas por esta crisis del acero para poner en marcha conjuntamente planes de dinamización comarcales solicitándoles que incluyan en los mismos los trabajos que viene desarrollando la ponencia parlamentaria

porque deben ser comarcas que contengan criterios objetivos para su clasificación como desfavorecidas porque

de recuperación y de restauración por último y sin que deje de tener su relevancia por citarlo al final

que se debata sobre el sector del acero cuando es euskadi la principal afectada por una crisis la lógica exige que los responsables de euskadi sean

solo desde la participación directa de la administración directamente implicada se podrán abordar los problemas con el conocimiento sensibilidad y con la complicidad que esos problemas y especialmente los de las plantas de acero

nos ofrecimos a negociar como no podía ser de otra manera y el fruto de tal negociación no es sino la enmienda de transacción que hemos firmado con el partido socialista y con bildu en la que se ha aceptado por un lado la presencia del gobierno vasco en los foros del acero como les comentaba hace un segundo

que son fundamentalmente las que se dan en estos casos sean devueltas en caso de cierre o deslocalización siguiendo además los criterios que ya establece la propia unión europa y es que hemos llegado a este acuerdo porque desde el principio me he sentido en el grupo parlamentario eaj pnv que represento

que tal situación está provocando en trabajadores y trabajadoras y sus familias

de apoyo a todos y todas los afectados una clara mayoría de apoyo a buscar entre todos soluciones y una clara mayoría de apoyo también al gobierno vasco

señalo el lehendakari y ante esa necesidad de buscar un amplio acuerdo hemos tenido

no obstante y además de agradecer los esfuerzos y felicitarnos porque hemos emprendido un camino juntos no puedo por menos que comentar que en última instancia solo quedaba un pequeño escollo por solventar que no era otro que decir

actuaciones o como nosotros sugeríamos era que al gobierno se le pedía seguir poniendo en marcha actuaciones

a pesar de que todo el mundo sabe que ya está en marcha la coordinación del sector con las administraciones y los sindicatos

hemos aceptado la transacción porque hemos entendido que es mejor como ya he dicho

se han volcado en el asunto desde el minuto uno obsesionarse con no escribir lo que en las portadas de los periódicos es obvio pues bueno

sutilmente enrevesado pero no lo suficiente para evitar no suscribir un acuerdo

para las y los trabajadores en ere o en paro y en definitiva es bueno para euskadi

lo importante es que con este acuerdo sienta aliento para continuar su trabajo como el de hoy mismo de la consejera de desarrollo económico reuniéndose

en definitiva lo importante que proponemos conjuntamente medidas a tomar para avanzar en una solución

que no preguntemos si estamos plenamente de acuerdo sino tan solo si marchamos por el mismo camino que es lo que yo creo que hoy

gracias señora presidenta buenos días de nuevo buenos días señora tapia agradezco profundamente su presencia aunque no me escuche

en el debate anterior pero ya nos han explicado precisamente estaba tratando estos asuntos señor tellería ha sido muy interesante la relación cronológica de cómo se ha debatido cómo se ha llegado a los acuerdos punto por punto con todo lujo de detalles pero yo pensaba que nos iba a contar

nos iba a contar un poquito cómo se iban a llevar a cabo punto por punto esos puntos de la enmienda yo pensaba que sí

en la comisión de la señora tapia yo me quedé más bien con otras palabras porque yo le pregunté porque si el problema es de la tarificación eléctrica si el problema es de la competencia desleal que nos hacen desde otros países productores de acero

y nos castiga aquí en sestao y en zumárraga y usted me contestó que era una

la inversión que iba a llevar a cabo en asturias que era una decisión cortoplacista que usted no compartía yo no sé si esos son buenos argumentos para sentarse luego a negociar con la empresa y pedirles que nos abran

nos dijo también que tenía un plan que les iba a trasladar un plan esperemos que en los próximos días

y compartir con la empresa que efectivamente se reanuda la actividad pero no sé porque me da que esa alegría no nos la va a poder dar lo cierto es que a día de hoy está cerrado sí es cierto también que nos dicen que no se van a

puestos de trabajo directos pero sí se perderán seguramente y muchos puestos de trabajos indirectos y vamos a perder una importante fuente

no es este el momento de las críticas yo creo que hoy es el momento de prestarle nuestro apoyo de apoyar entre todos esta moción y que salga adelante esperemos por unanimidad para que puedan poner en marcha todas las medidas que se contienen en ella de la misma manera que ocurrió la semana pasada hace dos semanas en el congreso de los diputados en madrid hablando de temas similares donde

un acuerdo de todos los grupos en torno a una propuesta del grupo nacionalista vasco que afecta a este asunto me gustaría efectivamente que por eso

esta propuesta fuera aprobada por unanimidad

es posible que grandes de los problemas y así cuando comparecieron los trabajadores

del ministro soria del gobierno de españa y de las tarifas eléctricas que eran desastrosas eran un horror

que el tema de la tarificación eléctrica era competencia exclusiva del gobierno del país yo pensaba que era una cuestión legislativa que se podía abordar desde el congreso de los diputados

quién ha propuesto eso y desde luego los grupos tienen abierta la puerta para presentar esas modificaciones que sean reales para que efectivamente podamos hacer a los problemas que tiene nuestra industria siderúrgica muchas gracias

es que este el camino no el camino que planteaba el señor tellería

a ese caminar juntos para solucionar los problemas

y los que están he hecho una diferencia ante los que se están se actúa lo que queremos es que se prevenga lo decía iker casanova prevención

que se plantean y que son conocidos prevención y actuación pero también en actuación en los problemas que hoy con esta crisis

un trabajador de zumárraga respondiendo que ya no trabajaba

porque era de contrata esto mismo

a los trabajadores de acb sestao hay trabajadores de contratas que no trabajan

porque si no llegaremos a intentar ayudarlas cuando mueran es decir su actividad es en enero es el momento de invertir es el momento de fijar es el momento de ayudar de leer cuál es su posición en el presente y ayudar para que tengan futuro porque sufren

quizá esas son las diferencias señor tellería cuando manifestamos el tema de qué se hace con respecto a qué se debería hacer humildemente

y creo que es la asignatura pendiente porque desgraciadamente hay una situación de cambio a la que debemos más

desde los gobiernos y también desde estas cámaras y es la globalización sus efectos nuestra operatividad en la economía

es decir ante problemas más complejos de los que eran hace veinte años y que requieren

a esa disposición de planes para que de pronto si pasa algo debemos de tener las medidas adecuadas para que adoptemos a eso es a lo que hemos venido los socialistas hoy proposición no de ley y aprovechando de que está señora consejera lo decía antes justo

de los recortes nos asusta el camino de no ejecutar lo ejecutable no sé si los datos que le voy a dar

se han dejado de gastar según lo que nos comentan los estudiosos presupuestarios

por ciento de su presupuesto en su departamento en el departamento de desarrollo económico y de ellos el grueso corresponde

y trece al fondo de innovación me comentaba usted en la comparecencia no se preocupen tienen destino lo decía de alguna manera para nosotros el destino es ahora actuar y por eso en esta

nuestra disposición clara asumida por todos es mire si ustedes necesitan recomponer de nuevo los presupuestos para dar respuesta efectiva a los problemas que tenemos

inguruko proposamena eta besteak etorriko direnak no seremos nosotros los que digamos que no se ha hecho nada ni somos amigos de negar el pan y la sal ni de pensar que hacer oposiciones u oponerse por principio a todo

y esas cosas están ahí lo que entendemos que nuestra labor es no criticar todo sino criticar lo criticable o lo que se hace mal efectivamente

criticar la actitud del gobierno vasco porque ha venido tarde

una actitud proactiva sino reactiva y como muestra de ello dos ejemplos uno referido

antes de que se produjera la primera reunión entre la consejería y el comité de empresa

su ausencia porque era consciente del pequeño problema que se le ha creado con el cambio del orden de los puntos

de acb precisamente entre otras cosas porque ayer yo también estuve reunido con el comité de empresa pero no tardé cuarenta días

que se notificó la situación de cierre de acb me puse en contacto con ellos para concertar una cita y supongo que si hubiese sido consejero o consejera me lo hubieran dado de forma inmediata como soy un humilde parlamentario tardaron unos días pero desde luego no cuarenta en el caso de zumárraga si en este caso reprochamos una

en la reacción que debe ser de carácter más sensible que es dirigirse en primer lugar y con urgencia

esa tardanza anterior se pasó a una hiperactividad en la cual se reaccionó se quiso dar la imagen de que se reaccionaba muy rápido pero para ellos se desempolvó informe de viabilidad que estaba caducado y se presentó como un producto fresco algo que realmente ya no tenía demasiada viabilidad tal y como quedó en evidencia por la declaración de la propia empresa y los sindicatos por tanto creo que

puesto solo estos dos ejemplos podría poner otros más pero no hay más que ver por otro lado precisamente

sindical vasco que ha convocado para este día veintitrés una manifestación en demanda de una política industrial real y cuando se pide una política industrial real lo que uno deduce al escuchar esa demanda

quizás existan una buena política comunicativa una buena política de ventas una buena política

como nos muestran casos como este que decía que deberían haberse atacado con anterioridad a que estallaran en forma de cierres esa manifestación del día veintitrés desde luego contará con la presencia de eh bildu porque compartimos ese mensaje compartimos ese discurso

ello no es óbice como decía que por encima de estas querellas

articular como de hecho se ha articulado una batería de medidas que creo que recogen básicamente todo lo que los diferentes grupos hemos podido percibir

recogen más o menos un estado de la materia un estado de las alternativas más o menos de carácter completo porque precisamente ha sido un trabajo de elaboración colectivo entiendo que es un buen punto de partida aunque evidentemente algunas de las propuestas aquí

que tienen nuestra crítica nuestra posición en aquellas cuestiones que consideramos que son erróneas pues también tendrán los diferentes agentes implicados o emplazados

y puedo respetar de alguna manera no me parece lógico unas críticas

las críticas son subjetivas la criticas depende la manera de ver o de la manera de intentar ver o que los demás vean bueno cada uno hace lo que señor arbulo solo una cosa

y se lo voy a aclarar a mí no me corresponde explicar cómo se va a gestionar una resolución de esta cámara cómo seguramente no le va a corresponder explicar al parlamento español cómo se va a gestionar

porque le puedo decir a usted usted puede explicarme cómo va a gestionar lo de la reducción de las tarifas eléctricas el sustituto del ministro soria

señor casanova le agradezco la actitud positiva la actitud constructiva

que el gobierno venía haciendo cosas también agradezco al señor azkue que al menos en la réplica

no sé si porque estábamos hablando de amor o porque ya ha llegado la consejera y entonces quería aprovechar pero en cualquier caso le agradezco porque a la primera el gobierno anda tarde y mal

aparenta más que hace hombre es que no sé parece que es usted de esos malos meteorólogos que saben explicar lo que ha ocurrido y que echan culpa a su colega meteorólogo que no ha sido capaz de prevenir

prevenir sabe usted que llevábamos

para pedir cosas que nos pueden arreglar en madrid como las tarifas eléctricas sabe cuánto tiempo llevamos trabajando ese tema sabe cuánto tiempo tenemos conciencia y el gobierno tiene conciencia de que ese es un problema estructural muy serio para el sector del acero

pueden provocar la caída como está ocurriendo es que también hay que mirar a lo que ocurre fuera no solo lo arreglamos con dentro

si tanto habíamos prevenido cuántas enmiendas se presentaron desde su grupo parlamentario a los presupuestos

en el municipio de zumárraga que tenían que ver con el arreglo de arcelor cuántas habíamos previsto que iba a ocurrir

es decir puestos a criticar pero yo insistiré insistiré hoy espero que

se va a apuntar espero que el señor maneiro de upyd también se apunte

al sector esto hace relevante que nos hayamos puesto de acuerdo cediendo un poco unos y otros

esto es la política esto es hacer acuerdos y esto le tiene que servir de alas también al propio gobierno para decir tengo el aliento de todo el parlamento unánimemente

habrá que esperar cómo gestionan ellos la resolución de aquí cómo gestiona la unión europea

y cómo gestiona el gobierno español lo que le estamos pidiendo desde aquí muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

efectivamente señor telleria el tono es mucho más amable el de todos que en el debate anterior pero no porque esté la consejera sino porque aquí lo que queremos es cerrar las filas en torno

que tiene que dirigir sus actuaciones yo creo que hemos sido todos muy duros

una lástima que no nos haya podido oír pero desde luego que tendrá a cualquiera de sus compañeros de grupo que le explicarán qué es lo que se ha hecho y se ha dicho aquí

y ya sé que no es su función precisamente decirnos cómo se va a llevar a cabo la moción

y como le suelo ver habitualmente y le oigo en sus intervenciones

y a veces parece más del gobierno que de uno de los grupos parlamentarios pensaba que hoy iba a continuar con esa dinámica y ya veo que no pero desde luego no era mi intención decirle qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer muchas gracias

sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor consejero

quiero trasladarles a todos ustedes resumida la muy interesante recomendación general del ararteko uno barra dos mil dieciséis de veintiséis de enero

energética en euskadi y a partir de esta recomendación y de las diferentes aportaciones realizadas por los diferentes grupos la transaccional que finalmente hemos firmado algunos grupos de esta cámara en pleno siglo veintiuno existe cada vez en euskadi que se encuentra ante serias dificultades para poder mantener una temperatura adecuada en su casa durante los meses fríos en concreto

de la población la encuesta de necesidades sociales dos mil catorce sobre pobreza documento que elabora el departamento de empleo y políticas sociales de este gobierno

en euskadi incorpora dos datos que han sufrido un incremento significativo en el periodo dos mil ocho dos mil doce el número de personas que tienen problemas para mantener su hogar a una temperatura adecuada durante los meses fríos ha alcanzado en dos mil catorce a doscientos treinta y cinco mil quinientos veintiséis personas

de servicios energéticos en el hogar incluyendo agua luz o teléfono afectó a treinta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco personas frente a las treinta y cinco mil ciento noventa y uno de este indicador es conocido como pobreza energética principalmente aparece como una consecuencia de la carencia de recursos económicos suficientes pero también

o del excesivo precio de los recursos energéticos la lucha contra la pobreza energética constituye una prioridad social que debe ser evaluada

ámbitos sociales se trata por lo tanto de poner en marcha medidas acciones específicas que acompañen a las políticas públicas e iniciativas sociales ya existentes con el objetivo de reducir y paliar los efectos de este fenómeno que afectará

invierno la pobreza energética se caracteriza en particular por la escasez de recursos económicos de las personas para poder acceder a unos estándares básicos de energía en sus hogares la energía es un bien común esencial e indispensable que permite a la ciudadanía tener una vida digna y que tiene naturaleza

de una vivienda adecuada los elementos específicos de este fenómeno tienen en cuenta que la precariedad de recursos energéticos no está únicamente relacionada con la situación

de las personas la necesidad de energía está estrechamente vinculada con las condiciones objetivas de los hogares también con las condiciones del mercado de suministro

no afecta únicamente a las personas con menor renta sino que puede extender sus efectos a otros colectivos cuáles son los factores que tienen incidencia

energética el incremento de la factura energética la crisis económica y la reducción de la renta de las personas el incremento en el consumo energético domestico obsolescencia energética del parque de edificios y viviendas y además destaca el ararteko la oportunidad de las energías renovables y de la gestión energética

a las políticas sociales destinadas al pago de la factura energética donde señala acertadamente que en especial las ayudas de emergencia social

a gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario necesarios para prevenir evitar o paliar situaciones de exclusión social el sistema

evidentemente para reducir el riesgo de exclusión energética de forma estructural señala también esto es importante que sin embargo los datos expuestos en la encuesta

para las dudas a pesar del régimen de ayudas sociales continúan existiendo personas y familias sometidas al fenómeno de la pobreza energética

cuáles son las consecuencias de la pobreza energética las consecuencias son múltiples y variadas tiene efectos sobre la salud

de los ciudadanos tiene efectos para los consumidores más vulnerables tiene también efectos

ambiente en muchos casos la ineficiencia térmica de los hogares está dando lugar a un sobre coste añadido que no solo tiene consecuencias económicas o sociales sino que perjudica también el medio ambiente tiene consecuencias por lo tanto variadas y múltiples este fenómeno conocido como pobreza energética por tanto les pide una respuesta específica un plan de acción concreto para tratar de prevenirla y paliar sus efectos concretos un paso importante para la toma en consideración de este problema energético lo ha dado

dirigidas a regular el sector energético y promover medidas de ahorro y eficiencia energética en las que expresamente se considera el fenómeno de la pobreza energética no me pararé en ellas pero dos de estas directivas han sido también incorporadas

a este fenómeno en euskadi hasta hace pocos años la pobreza energética ha sido un fenómeno relativamente desconocido existía pero seguramente

de que efectivamente existía hoy nadie duda de que existe pobreza energética en euskadi también evidentemente en otras comunidades autónomas pero

ciudadanos vascos de esta comunidad por lo tanto la pobreza energética ha venido adquiriendo mayor entidad en los últimos tiempos

importante a pesar de ello hasta la fecha las administraciones públicas vascas no han sido capaces de desarrollar una estrategia global específica

a la pobreza energética señala que no han sido capaces a nuestro entender pensamos que el conjunto de las administraciones públicas no han querido a este problema o al menos no han hecho todo lo que deberían haber hecho

y eso a pesar de que en este parlamento especialmente durante los últimos dos o tres años han sido varias las iniciativas que han planteado esta cuestión podemos

más recientes llevadas a cabo hasta la fecha para responder de forma especifica a la pobreza energética en euskadi algunas cosas se han hecho

pero es evidente que han sido y están siendo claramente insuficientes

medidas estructurales para paliar la pobreza energética dentro de las políticas sociales medidas estructurales para prevenir la pobreza energética mediante políticas de rehabilitación

existentes medidas estructurales para prevenir la pobreza energética mediante políticas de información y asesoramiento a los consumidores energéticos y otro tipo de medidas además en este parlamento se han debatido unas cuantas iniciativas parlamentarias

pues han sido incumplidas a pesar de haber salido aprobadas por parte de este gobierno pero es cierto que durante los últimos tiempos ha habido diferentes grupos que hemos planteado este asunto porque nos parece un asunto de extraordinaria

el ararteko señala una serie de principios a tener en cuenta en los planes de acción contra la pobreza energética principio de especialidad de la lucha contra la pobreza energética

de los colectivos vulnerables principio de garantía de acceso a unos suministros energéticos básicos para la ciudadanía principio de prevención de la exclusión energética principio de ahorro y reducción en el consumo principio de sostenibilidad de las medidas principio de intervención pública principio de concertación social

ciudadana y a partir de ahí el ararteko plantea una serie de propuestas de actuación y recomendaciones contra la pobreza energética en concreto en tres ámbitos en el ámbito de regulación del sector de la energía y de las personas consumidoras más vulnerables

el establecimiento de un plan de lucha contra la pobreza energética en euskadi y la definición del consumidor energético vulnerable susceptible de padecer pobreza energética

vulnerable en concreto garantizar el suministro de energía a los colectivos más vulnerables y el derecho a la información adecuada desde la perspectiva del consumidor más vulnerable medidas para mejorar la eficiencia energética en los hogares y edificios afectados por pobreza energética llevar a cabo auditorías energéticas

más vulnerables estudio de la eficiencia energética del parque de viviendas de protección pública ayudas a la rehabilitación energética dirigidas a los colectivos

ayudas de emergencia social dirigidas a la eficiencia energética de los hogares afectados por la pobreza energética y vinculación de las ayudas al ahorro energético

por el señor consejero hace algunos días en este parlamento nosotros presentamos una moción en la que básicamente lo que pedíamos al gobierno es la elaboración y la presentación en esta cámara antes de la finalización del actual periodo de sesiones de una estrategia integral para hacer a la pobreza energética en euskadi una estrategia integral

por hacer y a la vista también de las interesantes aportaciones realizadas por los diferentes grupos hemos finalmente firmado una transaccional una transaccional que creo que es muy razonable y que incorpora lo que pensamos que es lo que debe hacer el gobierno

insta al gobierno vasco a establecer en el actual periodo de sesiones indicadores sobre la pobreza energética en base a los cuales se realice un diagnóstico de las personas

en marcha hasta el momento dos en base al diagnóstico anterior a que elabore y presente en el parlamento antes de la finalización del actual periodo de sesiones una estrategia

en los argumentos y las propuestas de actuación de la recomendación del ararteko y en la resolución aprobada

en euskadi relacionada con la lucha contra la pobreza energética en concreto la número cuarenta y dos incumplida por el gobierno vasco y que decía exactamente lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que establezca una política integral de lucha contra la pobreza en el ámbito familiar

sectoriales de la pobreza jóvenes mujeres mayores pobreza energética etcétera y finalmente instamos al gobierno vasco a elaborar en cumplimiento de lo recogido en las directivas europeas un marco normativo apropiado

vulnerables y con el objetivo de darles protección defender ante las empresas energéticas la obligación de asegurar unos mínimos de electricidad y gas

en el ámbito de nuestras competencias esto es todo lo que proponemos creo que es un buen planteamiento creo que sería un

que este parlamento pudiera aprobar esta transaccional conel mayor número de votos posible seguramente el grupo nacionalistas vascos no vote a favor de esta iniciativa pero creo que si somos capaces de instar al gobierno vasco a hacer todo esto y a presentar esa estrategia integral en esta cámara cuanto antes

en un asunto que interesa cada vez más a los partidos políticos y desde luego al conjunto de los ciudadanos vascos nada más y gracias a los firmantes de esta transaccional y gracias también a los grupos que finalmente vayan

dauzkalako no podemos olvidar que el mismo modelo energético influye directamente en las causas que llevan a padecer pobreza energética el mismo ararteko dice en su resolución que el coste de los servicios energéticos ha favorecido en lugar de su ahorro asimismo destaca la situación del parque de viviendas construido un parque que en lo que respecta a las nuevas exigencias técnicas de eficiencia

al igual que eh bildu el ararteko también ve como una oportunidad la utilización y el aprovechamiento de las energías renovables y la gestión energética descentralizada no solamente por su claro beneficio medioambiental sino por la repercusión

por tanto si queremos abordar la problemática de la pobreza energética de manera eficaz no lo hagamos simplemente teniendo en cuenta una de las causas lehen

direla son personas que no pueden garantizar una temperatura

y eso sin duda tiene unas consecuencias nefastas para su salud y hablamos tanto de secuelas físicas problemas cardiovasculares o respiratorios como de secuelas y problemas psicológicos esos consumidores y consumidoras vulnerables son personas que reciben un salario

parados de larga duración pensionistas que reciben una jubilación miserable o los que se quedan fuera del sistema de protección social esos son

los que con una sola fuente de ingresos tienen que mantener en muchas ocasiones a más de una unidad convivencial por eso a eh bildu le parece conveniente

siempre presente a estas personas para evitar así

en una consideración que el ararteko también ha hecho nos estamos refiriendo a las dos directivas comunitarias para regular las normas comunes del mercado energético del sector de la electricidad que es la dos mil nueve barra setenta y dos y

tenemos que recordar que estas dos directivas comunitarias ya recogen ciertas obligaciones de servicio que corresponde aplicar a cada uno de los estados miembros por eso nos parece conveniente elaborar un marco normativo apropiado definiendo los clientes las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad para poder darles la protección que merecen poder imponer a las empresas energéticas la obligación de asegurar un mínimo de electricidad y gas beraz zuzentarau horietan

aldatu nahi duguna besteak beste el señor maneiro ya nos ha hablado de una enmienda transaccional que han firmado tres grupos no me voy a detener en este momento a explicarlos porque ya lo ha hecho pero sí decir que ciertamente en el punto número uno se recoge lo que

en nuestro primer punto de la enmienda a la totalidad como decíamos esos indicadores

energética y un diagnóstico de esas personas que están en esa situación para así poder actuar en el punto número dos se habla de esa resolución del ararteko que también hemos dicho que

aprobada sobre la pobreza energética en el pleno monográfico del siete

pues cómo no estamos de acuerdo aprobamos y apoyamos esa enmienda y además fuimos los que propusimos ese pleno

las dos directivas europeas que acabo de explicar y que se recogían también en nuestra enmienda a la totalidad en el segundo punto por tanto apoyaremos esta

todos efectivamente la pobreza energética vuelve a formar parte del debate parlamentario en esta ocasión trae el señor maneiro una moción a consecuencia de una interpelación que

más de cinco millónes de ciudadanos no pueden calentar sus hogares en invierno así empieza el estudio desarrollado por la asociación de ciencias ambientales y presentado esta misma semana en madrid y obviamente no son cinco millónes de ciudadanos vascos pero euskadi no es una isla señor consejero y hay muchos vascos y la cifra va creciendo

en esa agenda vasca que ustedes tantas veces nombran y que sin embargo a este tema le han quitado importancia hay tres factores determinantes como ya se han dicho aquí

los bajos salarios y la consiguiente caída del poder adquisitivo

la subida de los precios de la energía y el exceso de consumo de energía de las viviendas de baja calidad y en euskadi como le digo lejos de ser una isla este problema existe en este parlamento hemos hablado no dos ni tres veces

últimos años sobre esta nueva cara de la pobreza ha costado el reconocimiento de esta realidad por parte del gobierno en demasiadas ocasiones fue negado que esto sucedía y por eso hemos tardado tanto en empezar a actuar cada día conocemos más estudios más informes y más datos sobre la realidad de los hogares en toda españa y también por supuesto en los hogares vascos normalmente

por las organizaciones que trabajan en el campo de la pobreza quienes trabajan con los colectivos más vulnerables hicieron hace tiempo una llamada de atención a las administraciones públicas

gestionados desde el tercer sector debemos reconocer que aunque ayudan no solventan ha cambiado el perfil de solicitante aunque muchos factores siguen coincidiendo cuatrocientos mil euros que si no es por el grupo parlamentario socialista hubiera habido cero porque ustedes seguían poniendo

aquí en esta cámara se ha reconocido que no existe una base de datos de los hogares vascos en riesgo de este tipo de pobreza al mismo tiempo se ha repetido la idea equivocada

y la realidad está muy lejos de esto las organizaciones que trabajan en este campo como le digo tienen necesidad de pagar facturas a aquellas familias que llegan y les dicen

y hay que ser capaces de poner en marcha medidas que puedan evitar llegar a la situación de impago de facturas algunas se han empezado a hacer pero como le digo tarde

que tardó tanto en llegar que ni siquiera pudo ser gastada en su integridad y parte fue devuelta a las arcas públicas de las que salieron porque algo firmado en febrero no llegó hasta

que no fue entregada tampoco a tiempo hubo que hacer una pregunta al gobierno en un pleno de control para que se acelerara el proceso acusando a la organización que debe gestionarlo de no entregar un informe que hasta yo lo tenía y ante este problema existen diferentes posicionamientos mirar a otro lado que es lo que hizo su gobierno hasta que fue obligado a empezar a trabajar en él plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas estructurales que remedien situaciones dramáticas

consensos y por supuesto con una legislación los socialistas creemos

y contra la pobreza energética propuesta de ley que ya hemos presentado en el congreso de los diputados y que ya ha recibido las primeras enmiendas entendemos la necesidad de esta ley como una propuesta socialmente justa

para recuperar la dignidad perdida de millónes de personas y aunque hoy parece que este tema se le ha respondido a través de un consenso bastante amplio en esta cámara

para no aprobar una enmienda que tampoco pide más que que se cumpla lo pactado en este parlamento que son las resoluciones de aquel pleno que se puedan

en europa y que se haga un diagnostico de la situación a partir de los cuales tengamos los indicadores tengamos los datos y así el gobierno incluso podrá más fácilmente poner en marcha políticas que puedan paliar este problema por parte del grupo parlamentario socialista siempre hubo

porque a partir de ahí existe como digo esa partida presupuestaria pero es verdad que con esto no vale reconocemos que probablemente euskadi

si los comparamos con otras comunidades autónomas pero también es justo decir que el sistema de protección del que nos hemos dotado los vascos y al que miran la mayoría de las comunidades autónomas tampoco es comparable a ningún otro no por eso una cosa justifica la otra

las familias que hoy acuden a la ventanilla de cruz roja han cambiado de perfil son familias que sí tienen una nómina y que no están en riesgo de exclusión social

que ustedes plantean como solución pero que sin embargo no pueden pagar las facturas este parlamento

otra cosa es que el gobierno mire para otro lado pero el siete de noviembre de dos mil catorce celebramos un pleno monográfico sobre pobreza

con esta realidad que ya ha mencionado el señor maneiro y que además ha sido recogida en la enmienda transaccional

que es justo pedir al gobierno que cumpla con los mandatos parlamentarios tampoco nos sorprende que no lo hagan la mayoría de las proposiciones no de ley en las que ustedes no participan en la votación

como ya decíamos en aquel pleno debemos ser capaces de recuperar la calidad de vida de las familias y de las personas y mientras nosotros seguimos aquí debatiendo sabemos

con lo que ha trasladado el problema al sector eléctrico a los consumidores más vulnerables y a las energías renovables

que este asunto debiera estar lejos de una defensa ideológica y debiera ser un asunto en la agenda política de todos y cada uno de los partidos hoy no sé qué número exacto hace

la pobreza energética en este parlamento vasco lo que nos termina de sorprender es que cuando ya lo hemos debatido tantas veces

cuando tenemos una organización como cruz roja que tiene datos conoce a las familias y está en la calle y de primera mano está ayudando a las familias por qué este gobierno todavía no quiere al acuerdo de todos los grupos parlamentarios que dicen que esta realidad necesita una respuesta y una respuesta real que vaya más allá de la coyuntura o de la ideología hay familias que no pueden pagar

ni las facturas de la luz ni la factura del gas y esto es algo más que injusto

sociales a las que todas las familias tienen que tener derecho vivimos en una comunidad autónoma con inviernos más que fríos y aunque es verdad que en esta ocasión se ha contado con los cuatrocientos mil euros en el mes de febrero

lo que tardaron el presupuesto anterior en ejercerlo lo que sí que nos gustaría es que este tema venga alguna vez a propuesta del gobierno con una iniciativa de una política concreta y en ese momento nos creeremos que se creen la pobreza energética y que están dispuestos a ponerle una solución

duelako esta iniciativa esta moción que debatimos hoy en este pleno viene a colación de una interpelación presentada por el señor maneiro

veintiséis de enero de dos mil dieciséis en la moción inicial se solicita la elaboración de una estrategia integral esa es la petición

algunas cuestiones aunque sí se hace referencia a la elaboración de una estrategia integral para la presentación también en esta cámara

parlamento en numerosas ocasiones y es una cuestión importante

personas y por eso también hay que tratarla con un rigor importante esto es un fenómeno que aunque siempre ha podido estar ahí ha salido

de la crisis económica y por los propios efectos de la crisis

en estos momentos como se ha dicho aquí por pobreza energética entendemos la escasez de estándares básicos de energía en los hogares que lleva a

serias para acceder a servicios energéticos los servicios

bienestar de las personas en la salud de las personas en su calidad de vida

y es una cuestión en la que cómo no porque son los más afectados hay que tener en cuenta a las personas o los colectivos que están en una situación de especial vulnerabilidad

y que debe de ser abordada desde los distintos ámbitos e instituciones obviamente dentro del ámbito competencial

institución en el ámbito de la unión europea todos conocemos y en la propia recomendación del ararteko se hace un repaso exhaustivo de las propias directivas

y promover medidas específicas de ahorro y eficiencia a nivel estatal también se han hecho avances importantes como todo lo que tiene que ver con el consumidor vulnerable y bono social

eléctrico contempla la figura del consumidor vulnerable es una medida para garantizar la protección adecuada a través del derecho

también hay que citar aquí porque creo que son políticas muy importantes

son las políticas de rehabilitación de edificios y lucha contra la pobreza energética que se han concretado en una real decreto ley siete barra dos mil quince del treinta de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana

y es el objeto de la iniciativa de hoy poner deberes concretos al gobierno vasco dentro de su propio ámbito competencial tenemos ya medidas en el ámbito social o un sistema de protección articulado que intenta paliar

las situaciones puntuales o no puntuales

y creo que esto tiene un efecto positivo en paliar las consecuencias de la pobreza energética y también

de rehabilitación de las edificaciones existentes como en otros ámbitos

cuáles son sus respectivos ámbitos competenciales en donde hay posibilidades de actuación

aprobado iniciativas en relación a esta cuestión tener una foto real de la situación con un diagnóstico de las personas en situación de pobreza y también una evaluación de las medidas ya que se han podido poner en marcha por parte del ejecutivo

nos parece también interesante y lo recogíamos en nuestra enmienda tener en cuenta

establecidas en la propia recomendación del ararteko las bases para el debate social sobre la pobreza energética en euskadi por lo tanto también hubo una resolución concreta y resoluciones aprobadas en el debate monográfico del siete de noviembre de dos mil catorce

y seguir reforzando aquellas políticas para que la pobreza energética tenga una incidencia

más vulnerables en consecuencia hemos firmado esta enmienda de

se le ponen deberes al gobierno y espero que el gobierno vasco pues dé cumplida respuesta a los mandatos que una vez más en esta materia

como dice el informe del ararteko la pobreza energética es una cruda realidad enmascarada en muchos casos dentro de situaciones más amplias de pobreza y precariedad va en la misma línea que el último informe sobre pobreza energética en españa donde dice que la pobreza energética no es un fenómeno aislado

zerbitzuak erabiltzeko aukerarik eza ere bada por lo tanto señorías estamos hablando de familias que no llegan a fin de mes que no tienen ingresos suficientes para cubrir lo servicios mínimos

desde hace dos décadas como bien se aprobó en el monográfico que ya se ha mencionado por los distintos parlamentarios

integral de lucha contra la pobreza en el ámbito familiar

pobreza energética porque es en la línea que ha estado trabajando este gobierno durante las dos ultimas décadas que tenemos

a este índice de la pobreza energética sí pero que también si miramos atrás tenemos mucho camino hecho también porque en el gobierno vasco desde hace dos décadas es fuerte con los débiles pero cómo medimos esta pobreza energética

que son los que hacen que esa cuestión de tiempo porque creo que todos trabajamos en la misma línea de

es en esta medición y en los problemas reales que existen para medir este índice

y en el reino unido que llevan desde los años ochenta trabajando con estos indicadores

yo creo que es bueno que tengamos claramente para saber a qué nos enfrentamos

que es un hogar que está en pobreza energética se dedica más del diez por ciento de sus ingresos a sufragar sus costes energéticos desde entonces se han propuesto diferentes definiciones alternativas algunas de ellas se han centrado en la proporción de gastos energéticos en relación al total de ingresos de los hogares

hay un segundo grupo que ha optado por indicadores basados en la media o mediana del gasto

en tercer lugar nos encontramos con definiciones basadas en un estándar de ingresos mínimos

resultaba de una cantidad superior a sus gastos energéticos reales

hay un cuarto grupo de indicadores definidos que han propuesto un indicador mixto que cruza precios energéticos e ingresos del hogar para ella solo aquel hogar situado en el cuadrante más desfavorable después de algunas ponderaciones entraría dentro de la categoría de pobreza energética

aún así todo cuando analizamos este documento y vemos cómo está

también lo han certificado de cómo efectivamente la realidad de euskadi es bien diferente aunque no deja de existir esos problemas pero tenemos en el índice el porcentaje si tienen aquí en la página cuarenta y siete en este porcentaje de los avales de pobreza energética por comunidades autónomas

que es el más aproximado a que en el dos mil trece el reino unido ha cambiado su indicador para medir la pobreza energética y ha escogido un indicador que está con las siglas lihc que se refiere a

de la energía lo más parecido que hacen estos economistas porque aquí en españa no hay esas estadísticas para poder hacer el mismo estilo que el reino unido

la comunidad autónoma vasca está con el cuatro coma noventa y tres es la más baja de todo el estado ya sé que esono implica que tenemos también aquí familias pero es que todo eso es por estas dos décadas de trabajo que llevamos haciendo

política estructural que el ararteko también lo dice tienen hasta seis indicadores donde está la comunidad autónoma que está bastante bien en casi todos de ellos es la menor bien y por qué ha sido todo esto por las medidas estructurales para paliar la pobreza energética dentro de las políticas sociales y esto lo dice

gracias a estas medidas estructurales para prevenir la pobreza energética mediante políticas de rehabilitación de las edificaciones existentes

y gracias a otras medidas directas como están todas las ayudas que ha presentado el partido socialista es decir tenemos un conjunto de ayudas

es una realidad que en el año noventa y ocho nuestras ayudas de emergencia social aparte de sujetar a la familia porque de qué estamos hablando estamos hablando de una familia que no llega a fin de mes será

por los estudios será por la prestación complementaria de vivienda será porque tiene poco sueldo entonces en esa definición de esa arista

ahí tenemos el gran problema que tiene ahora mismo europa para definir un indicador bueno ese problema que este mismo informe lo dice qué es lo que ocurre que en españa sí que hemos definido hemos trasladado esa directiva en el año dos mil trece con la ley eléctrica que hemos dicho quién es el consumidor vulnerable pero qué ha ocurrido

con lo cual en españa y se lo dicen perfectamente en este informe

y lo tiene aquí en la página siete este es el principal problema

deberán tener como referencia fundamental los hogares vulnerables y en eso estamos de acuerdo todos los partidos es decir aquellos con mayor probabilidad de incurrir en situaciones de pobreza energética para ello es preciso

un ejercicio que aún no se ha realizado en españa no hemos desarrollado los reglamentos

ese cliente vulnerable algo a lo que el partido socialista presentó en el congreso en el dos mil catorce y todos los partidos

y se lo cepilló necesitamos ese desarrollo ustedes en el punto tres dicen que lo hagamos nosotros pues me parece muy bien y hasta que el partido popular nos lo dice también háganlo ustedes pues ya lo haremos

como dice el ararteko también en su informe el estado ha recurrido al que lo ha intentado hacer que es cataluña

sino que ya el dieciséis de marzo ha salido la sentencia del tribunal constitucional y le dice oiga usted si usted quiere legislar qué es el consumidor vulnerable

eso es cosa mía y esa sentencia la tienen el dieciséis de marzo

nosotros hacerlo aquí encantados que nos lo diga encima el partido popular que dice oiga mire desde el año dos mil nueve he sido incapaz en españa de desarrollar esto desarróllenlo ustedes lo podremos hacer pero eso es un deber que tiene que hacer el estado español que el resto de partidos dice que sí pues porque estamos ahora en el buenismo y tenemos que hacerlo todo lo hacemos pero cuál es el problema de aquí el problema de aquí con el acuerdo que ustedes toman hoy son los tiempos y eso

cuál es el indicador básico ustedes mismos ya están bueno

y junio dos meses en dos meses tenemos que hacer lo que no ha hecho españa desde el dos mil nueve

y ahora lo ha cambiado es decir con un histórico ya de veinte años de trabajo y ahora nosotros aquí en dos meses vamos a ser capaces de hacer va a estar muy bien porque va a ser capaz

de pobreza energética cuál es el mejor para españa y para euskadi genial por qué porque el estado español no ha hecho nada

en este clima de buenismo nosotros con esa responsabilidad que nos caracteriza lo tenemos que decir y eso es imposible eskerrik asko

gracias presidenta señor carro el partido nacionalista vasco es capaz de eso y de mucho más no tenemos ninguna duda que si hay voluntad política

es capaz de resolver todos esos problemas y que el tiempo no es ningún problema si efectivamente hay voluntad política el pnv será capaz de demostrarlo no tenemos ninguna duda por cierto yo no sabía si efectivamente usted estaba hablando en nombre

del gobierno en todo caso pensamos que hay muchas cosas por hacer y deben hacerse

y no han avanzado en diferentes cuestiones por lo tanto se trata de recordarles qué es aquello que queda pendiente de hacer más allá de que algunas cosas se han hecho

sí ya a día de hoy nadie puede negarlo el gobierno vasco hasta hace bien poco lo negaba ahora ya no puede negarlo aunque eso sí minusvalora sigue minusvalorando este asunto se niega a comprometerse en determinadas medidas concretas que están señaladas en esa enmienda de transacción

echando balones fuera que otras comunidades autónomas españolas o el resto de comunidades autónomas están peor cierto es el resto de comunidades autónomas

vascos que sufren pobreza energética y eso en nuestra opinión es una barbaridad

a que resuelva esta cuestión al gobierno del pp se le podrían decir estas cosas y muchas más pero estamos en el parlamento vasco por lo tanto no utilicen

ese de que el resto de comunidades autónomas están peor sí ya lo sabemos también en esta cuestión están peor pero

vascos que sufren pobreza energética ha tomado medidas este gobierno para hacer frente a este grave problema

escasas y siempre deslavazadas no integradas en una estrategia integral parches

este gobierno ha tenido que ser arrastrado por los diferentes grupos parlamentarios de esta cámara para tomar medidas en relación a esta cuestión ha tenido que ser arrastrado porque si no por sí solo no era capaz de tomar una sola medida

por lo tanto bien a través de enmiendas a los presupuestos bien a través de determinadas proposiciones no de ley en este parlamento este gobierno ha tenido que ser arrastrado por los diferentes grupos porque por propia iniciativa no era capaz de tomar ni una sola medida muchas de esas iniciativas aprobadas en este parlamento han sido incumplidas por parte de este gobierno por ejemplo

que está incluida en esas propuestas de resolución aprobadas durante el debate monográfico sobre la cuestión y que aquí se la hemos recordado y está incluida también en esa enmienda de transacción la número cuarenta y dos no ha sido cumplida por parte

por lo tanto ya tiene un trabajo que realizar lo dice además lo dijo el propio consejero el presupuesto del año dos mil quince tuvo una dotación

vale insuficiente dice el propio consejero el propio consejero dice vale insuficiente fue una partida insuficiente y por qué no incluyeron una partida

ellos eran capaces de no incluir ni una sola partida ni un solo euro tuvo que ser otro grupo quien le dijera

que tienen que incluir ustedes para que puedan ser aprobados los presupuestos

también insuficiente lo dice y lo dijo el propio consejero

el departamento de empleo y políticas sociales se puso en contacto con las principales empresas energéticas es decir arrastrado otra vez por los grupos parlamentarios porque el gobierno vasco tiene muy buenas ideas pero parece ser que no es capaz de aplicar ni una sola tiene que ser arrastrado por los diferentes grupos un ejemplo más

gobierno no tiene iniciativa por lo tanto puede hacer más este gobierno evidentemente lo dice el propio ararteko en su recomendación cuando señala que los datos expuestos en la encuesta de necesidades sociales

para las dudas a pesar del régimen de ayudas sociales continúan existiendo personas y familias sometidas al fenómeno de la pobreza energética en invierno o cuando dice que a pesar de ello hasta la fecha las administraciones públicas vascas no han sido capaces de desarrollar una estrategia global específica

y el propio señor consejero también lo reconoció así durante el debate de la interpelación cuando señaló expresamente que todavía tenemos camino efectivamente quedan muchas cosas por hacer y algunas de esas cosas que quedan por hacer están señaladas en esa enmienda de transacción por lo tanto el problema

cuestión de tiempo no es cuestión de cómo medimos la pobreza energética el problema fundamental es llevar a cabo un diagnóstico tomar medidas estructurales para hacer frente a este

con voluntad política se pueden resolver todos los problemas y esto es lo que le ha faltado a este gobierno y para terminar con el permiso de la presidenta

el señor lehendakari reclaman un nuevo estatus reclaman nuevas competencias nosotros le pedimos a este gobierno que utilice las competencias que ya tiene

reales de los ciudadanos vascos y el problema de la pobreza energética es un problema real que afecta a

y a miles de familias dejen de pedir nuevas competencias y las que ya tienen en fin

bai eskerrik asko berriro brevemente en cuanto a los indicadores señor carro

en los indicadores que se recogen en la encuesta de pobreza y luego usted

del estado español con otros indicadores que parece que también da por bueno lo que no da por bueno es el informe del eve que hemos solicitado en esta cámara en más de una ocasión y que ustedes han votado en contra nos ha hablado de esa política estructural que se lleva a cabo desde hace

trabajando y que gracias a eso aquí en araba

estamos bien o no estamos tan mal como en el estado español para qué nos sirve esa reflexión señor carro de qué para qué nos sirve en qué ayuda eso a las personas que hoy mismo está en esa situación y que no pueden pagar la factura del gas sirve para algo no vamos a centrarnos en el problema que tenemos aquí y vamos a ver si le damos una solución la solución desde luego no es seguir con la misma política

porque si esa política va en esta dirección y los clientes vulnerables van en esta dirección que es lo que nos dice el ararteko

entonces habrá que cambiar de estrategia

quiénes son esas personas y habrá que buscar muy bien cuáles son las soluciones que es lo que pedimos o lo que piden los señores y señoras que han firmado la enmienda transaccional y ustedes lo único que proponen es meter en el mismo saco todo que es lo que dice

que dentro de esa política integral de lucha contra la pobreza pues también se desarrolle la recomendación del ararteko que dice unas cuantas

aquí lo que estamos viendo es que las políticas son las mismas no hay más compromiso no hay medidas nuevas no hay más presupuesto pues si vamos metiendo todo dentro de ese mismo saco algún día el saco

va a estallar no sé por qué considera usted que es inasumible lo que se presenta en esta enmienda de transacción por el tiempo

esta no es la primera propuesta que se trae sobre pobreza energética a esta cámara toda la legislatura se viene hablando de pobreza energética parece que ahora es cuando se dan cuenta que quedan dos meses y no da tiempo

creemos que es más una cuestión de voluntad y además por esa misma regla de tres pues seguramente no estaríamos metiendo enmiendas a las leyes o no estaríamos tratando las leyes en ponencia o no estarían llegando todavía leyes a este parlamento porque igual no va a haber tiempo no va a haber tiempo en dos meses de terminar estos trabajos la actividad se para

tranquilamente esa enmienda transaccional

vamos tampoco creemos que sea una cuestión de compromisos porque en muchas ocasiones han firmado

transaccionales con toda su buena voluntad seguramente a sabiendas de que el gobierno no las iba a cumplir por lo tanto pues tampoco nos parece otra excusa
a tener en cuenta sin más reiterar el apoyo a la firmada eskerrik asko blanco andrea

mire señor carro oportunidad número veintitrés ustedes no se creen el problema de la pobreza energética es que no se lo creen da igual los debates que tengamos da igual quiénes firmemos quiénes no firmemos

entonces no me venga con el cuento de los veinte años otra vez le tenemos que explicar que hay gente que tiene trabajo y no puede pagar la factura y que no pueden acogerse a las aes o esa gente no existe otra vez le tenemos que decir que la rgi

una ayuda para poder llegar a fin de mes es que yo no sé qué parte no entienden o no quieren entender a ustedes en el fondo les vino hasta bien que el grupo socialista les planteara la enmienda al presupuesto porque así se quitaron un problema mientras lo gestionan los de la cruz roja nosotros no hacemos nada

hombre hace dos años ustedes firmaron una proposición no de ley con nosotros

me está diciendo que el gobierno del pnv no ha hecho nada o sea nada aprobaron eso se lo dieron a la cruz roja y a verlas venir hombre

iba a intentar trabajar en solucionar el tema de la pobreza energética porque entiendo que usted comparte conmigo

mire señor carro el problema es que cuando alguien no cree en algo se le nota demasiado y ustedes no creen en esto

y nos quieren decir que resulta que si españa no desarrolla el indicador de quiénes son los clientes vulnerables

entonces ustedes cuando hablando de autogobierno de qué hablan no sé

para los socialistas el autogobierno es la herramienta que mejora la vida de los ciudadanos vascos para ustedes el autogobierno

y sabe qué pasa que hay gente dentro de la pobreza energética del pnv

y el autogobierno es una herramienta de todos y ustedes entienden pues como todo

a gusto y semejanza del pnv mire la pobreza energética es una situación real ustedes se encargaron de negarla cuando no les queda ya otro remedio que reconocerlo porque cáritas cruz roja naciones unidas

cuando ya todo el mundo ya no sabe qué escribir más sobre este tema

pero bueno que los vascos ya llevamos veinte años solucionando el problema pero qué problema si lo negaban

y cuando una vez más la oposición le trae a ustedes un pleno monográfico que trate el tema de la pobreza

una vez más a incumplirlo porque como no nace del pnv

pues yo les invitaría que tuvieran una reunión con la organización que gestiona el presupuesto de la pobreza energética que se les expliquen qué perfiles llegan a la ventanilla de la cruz roja que no son los que llegan al ayuntamiento

que hay familias que cobran mil euros y no pueden pagar cuatrocientos euros de factura

y existen y merecen dignidad y ustedes pasan de largo y se inventan pues excusa baratas

y el autogobierno es una herramienta de todos y debiera ser utilizada para solucionar o al menos mejorar la vida de los ciudadanos

nació para que los vascos dentro de nuestras competencias con los sistemas que nosotros nos hemos dotado que además reconozco que en el tema de política social es mejor que el de otras comunidades autónomas lo aprovechemos

y entonces señor carro dos años perdiendo el tiempo dos años retrasando la partida que les damos los socialistas para decirles por favor intenten arreglar esto

porque esto es coyuntural tráigannos antes de que acabe la legislatura una negociación para ver qué podemos hacer y solucionar este problema

que quedan dos años en el mejor de los casos porque no sabemos qué va hacer el señor urkullu

el partido de los ciudadanos qué ciudadanos los del batzoki o todos

ustedes no creen en esto y lo que es peor creen el sistema de políticas sociales lo han hecho ustedes

que los hemos dotado todos de esto que forma parte de la política vasca y esto lo hemos hecho no solo los nacionalistas ni solo los socialistas y los populares y hoy eh bildu y en su día batasuna que somos todos parte del mismo país

también tienen derecho a que les defendamos desde el escaño y desde la política de autogobierno ustedes niegan la existencia de la pobreza energética porque no saben cómo arreglarlo y si no llega haber cuatrocientos mil euros habría mucha más gente
y sin agua y ustedes son los responsables eskerrik asko rojo andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

de escapismo del partido nacionalista vasco del gobierno cuando tiene posibilidad de utilizar sus instrumentos pues pone excusas en este caso la excusa tan peregrina ha sido la de que estamos al final de la legislatura bueno que quedan dos meses no sabemos

de las elecciones porque un día nos dice que todavía queda mucho por hacer pero otro día nos dice que no pasaría nada si se adelantaran las elecciones yo creo que el gobierno

que hemos alcanzado es muy claro se le ponen nuevamente en una materia

deberes creo que a estas alturas ya sabemos cuál es el ámbito competencial de cada uno o este gobierno debería de saber cuál es el ámbito competencial en esta materia también y creo que tampoco hace falta decir que no hace falta tampoco animarle a este gobierno

excederse ese ámbito competencial porque mire este grupo también ha defendido por ejemplo una ley de vivienda

y cuando ha llegado y se ha aprobado la ley de vivienda pues se ha considerado conveniente impugnar aquellos puntos que suponían una vulneración

del país vasco por cierto ustedes hablan continuamente de recentralización de acoso a la autonomía vasca al autogobierno vasco pero luego

o el de la ley del fracking que le viene muy bien a este gobierno porque hizo todo lo posible

que vino por parte de la oposición por lo tanto aquí yo creo que ya transcurridos unos años de legislatura del partido nacionalista vasco ya nos conocemos todos y nos conocemos muy bien

el partido nacionalista vasco miren ustedes en este ámbito concreto tienen mucho que pueden hacer como en otras muchas cosas luego vamos a debatir los planes locales comarcales de empleo

al que luego me referiré y está como está efectivamente por lo tanto deje de hacer victimismo deje de hacer autocomplacencia dejen de echar las culpas a los demás

de los compromisos adquiridos con este gobierno también en cuanto a leyes aprobadas y de los veintinueve proyectos de ley que dijo el gobierno que iba a remitir a este parlamento

por lo tanto creo que el balance deja mucho que desear y las cifras puestas encima de la mesa las cifras de verdad

verán no sabemos cuál es el día de las elecciones pero que ustedes están ya en campaña lo han dejado perfectamente claro

voluntad política toda habla de problemas reales y nuevas competencias

resolver este tema tanto el de las tarifas eléctricas como el del consumidor vulnerable dígale al partido popular que nos la traslade y verá cómo

como para este caso todo el tema de la pobreza energética verá si efectivamente la sabemos desarrollar y no esperamos desde el dos mil nueve o al dos mil trece que ha aparecido el consumidor vulnerable a desarrollarla

claro que existe siempre ha existido el problema lo que le estamos diciendo es que son familias que no llegan a fin de mes que tienen un montón de

y la pobreza energética es una más no por mucho que

no es decir es una realidad que está ahí pero que hay que desarrollarla dentro de todo el sistema

ya sea de vivienda de eficiencia de cambio de electrodomésticos de ayuda de emergencia social que parece que hay como un totum revolutum esto no es algo del partido nacionalista vasco

de esta cámara y los que no estaban en esta cámara que han creído en un modelo y llevamos dos décadas con este modelo y eso es una realidad

ya sabemos que tenemos todavía mucho campo por hacer pero la realidad es que cuando miramos para atrás y es bueno saber dónde estamos el cuarenta por ciento de todas las ayudas que hay

de sus habitantes y la siguiente comunidad resulta que no llega ni a la mitad y tiene tres veces más y esa es la foto y esa es la realidad

y claro que esto no es lo mismo de año en año se ha ido aumentando esa protección y actualmente hay más de cuatrocientos sesenta y uno millónes

para que cuando les digo que en dos meses es imposible nos podríamos abstener o votarles a favor pero es que no es una realidad no es una realidad cuando estamos viendo en países que llevan ya con más de veinte años con estos indicadores el problema que hay real para definir claramente

en ese informe tienen seis centrémonos trabajemos en común todos los partidos por buscar cuál es el mejor índice

que sufren esta pobreza energética concreta claro voluntad política toda pero lo que no podemos pretender es engañar a la gente y decirles que aquí

lo van a tener todo la normativa que el estado no aprueba que ustedes dicen que la aprobemos nosotros cuando el dieciséis de marzo por sentencia del tribunal constitucional le ha dicho a cataluña que ni hablar con regular eso que es una normativa del estado

nos lo trasladan además es un problema real con el sector eléctrico tenemos verdaderos problemas reales en este país